para desde el procedimiento legislativo y a través de la iniciativa de los grupos parlamentarios que nos permite el reglamento de esta cámara

en lugar de hacerlo a través de un proyecto de ley y esta proposición de ley de modificación de la ley de turismo de euskadi en este caso tiene un doble objetivo por un lado dar un tratamiento específico a las modalidades de alojamiento turístico en el ámbito rural

completar también el tratamiento de la ley de turismo de euskadi en lo que respecta a las actividades de publicidad

no solo a las empresas turísticas sino también a los canales de intermediación en definitiva este segundo objetivo pretende la ampliación del ámbito de la potestad sancionadora a los canales de intermediación la ley trece

en su título quinto en los seis capítulos trata la actividad turística regulando los diferentes tipos de empresas y establecimientos la ley se centra en pormenorizar y establecer pautas generales

incluyéndose nuevas figuras alojativas y recoge también la posibilidad de compatibilizar diferentes tipos de establecimientos contemplando además las nuevas figuras de mediación en el desarrollo normativo de esta ley la ley de turismo se publica el decreto

isiltasuna mesedez de viviendas y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico en ese decreto

se expresa que la ley anuncia como una de las novedades en la ordenación del sector la regulación del alojamiento en viviendas particulares recuperando de esta manera una figura que a raíz de la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación ha ido abriéndose paso con gran empuje en los últimos tiempos y de ahí que el decreto aborde la regulación del alojamiento en viviendas y en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico

y con la finalidad de garantizar igualmente el principio de legalidad y la debida ponderación de todos los intereses afectados

se establecen condiciones y requisitos cuya exigencia respeta los principios de necesidad y proporcionalidad y no supone ninguna restricción injustificada de entrada en el mercado de las viviendas y habitaciones

se dice también en ese decreto dos mil dieciocho que no puede olvidarse que el alojamiento turístico se desarrolla en un entorno residencial en el que se hace preciso compatibilizar

a disfrutar de su vivienda sin especiales perturbaciones por eso ese decreto incorpora la posibilidad que tienen las comunidades de propietarios a prohibir la actividad alojativa de conformidad con la ley de propiedad horizontal

otorga a los ayuntamientos en relación con la ley de suelo y urbanismo del país vasco

de euskadi este decreto también de dos mil dieciocho establece a través de una disposición adicional la disposición adicional primera sobre el alojamiento turístico en el medio rural que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma los alojamientos que se presten en las viviendas de habitaciones de uso turístico situadas

o en zonas clasificadas como suelo no urbanizable los alojamientos que presten las personas agricultoras y ganaderas en los caseríos integrados en una explotación agraria y los alojamientos que se presten en edificios o construcciones que respondan

estos casos se regularán por establecido en la norma específica reguladora de los establecimientos de alojamiento turístico

y es ahí en esa remisión cuando tenemos que ir a la disposición adicional primera que nos lleva al decreto del año dos mil trece de dieciséis de abril de dos mil trece por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural

de aquel entonces no la de dos mil dieciséis relativa a los agroturismos y las casas rurales

exclusivamente porque en dos mil trece no se contemplaban esas nuevas figuras alojativas en el medio rural como es el caso de las viviendas de uso turístico o las habitaciones

el inicio de su tramitación de la ley de turismo lo que pretendemos en definitiva y en trazo grueso es que la actividad alojativa en el ámbito rural

desde la protección del medio rural y en el marco del desarrollo de un turismo sostenible social y medioambientalmente

en cuenta también la directiva de servicios como no podía ser de otra manera una directiva que permite limitar las restricciones de una actividad siempre

interés general y criterios de necesidad y proporcionalidad que en este caso podemos resumirlos como la preservación del entorno rural y su desarrollo sostenible

porque la comisión europea plantea que entre los tres problemas característicos que afectan al mundo rural cuya solución o no determinará en gran medida su futuro está en la presión del mundo moderno que se produce especialmente en las regiones rurales cercanas

o con fácil acceso a ellas en situaciones como estas la sostenibilidad del mundo rural

cuestiones cruciales la utilización del suelo la transformación del paisaje el debilitamiento del equilibrio ecológico la sobrecarga estacional de población debido al turismo

expone que el objetivo no es tanto la aceleración del desarrollo económico en zonas rurales como el necesario incremento de la protección del medio rural

que esta modificación de ley de turismo pretendía dos objetivos y el segundo

a los canales de intermediación que plantea la propia ley de turismo del año dos mil dieciséis este asunto

un tema menor el vigente artículo setenta y seis de la ley de turismo de euskadi sujeta la disciplina turística únicamente a las empresas turísticas a las que desarrollan una actividad turística de alojamiento o mediación y a los profesionales turísticos

a los llamados canales de oferta turística a plataformas inmobiliarias o medios de comunicación que realizan publicidad y para corregir esta omisión proponemos incluir en la

como sujetos susceptibles de sanción los tres tipos considerados como canales de intermediación los tipos de infracción serían dos por un lado la contratación de los servicios clandestinos previstos en el artículo noventa y cuatro punto dos

de modo que si se aprueba esta propuesta de modificación un canal de intermediación que incurra en alguna de las conductas sancionables podrá ser sancionado cosa que no ocurre a día de hoy y por otro lado se trata de incluir también en la ley como infracción grave y por ello sancionable la realización de publicidad o intermediación incluido el simple alojamiento de contenidos en internet cuando no se hace constar el número de registro

de posibilitar la exigencia de responsabilidades por las actuaciones de publicidad

de la oferta clandestina y de aquella que se realice omitiendo el número de inscripción registral con un importante grado de seguridad jurídica ambos asuntos la cuestión de las viviendas turísticas y habitaciones de uso turístico en el medio rural

son asuntos que integran en definitiva la modificación

son planteamientos que hemos hecho por seguridad jurídica mediante

legal una regulación legal y no de desarrollo normativo o reglamentario precisamente por esa seguridad jurídica este es el contenido de la proposición

trece de veintiocho de julio de dos mil dieciséis un contenido y una proposición que espero que hoy inicie que

en la tramitación correspondiente una tramitación que los socialistas vascos planteamos como abierta al diálogo abierta a la negociación

entendiendo que hay margen de mejora en la misma para hacer

y equilibrados los intereses que hoy se manifiestan como contrapuestos y que no satisfacen a ninguna de las partes afectadas en lo que a las viviendas de uso turístico

existen estoy convencida que los grupos parlamentarios sabremos convertirnos en catalizadores de la generación de un amplio y satisfactorio acuerdo

señor lehendakari consejeros señorías la proposición de ley que nos proponen para su toma en consideración consta de cuatro artículos una disposición

y tiene como única finalidad principal excluir

la prestación de un servicio de alojamiento temporal en las denominadas viviendas de uso turístico o en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico cuando dichas viviendas

caseríos que a su vez estén integrados en una explotación

de población de carácter rural esto dice el artículo

pero en este artículo se definen las viviendas de uso turístico concepto y ámbito de aplicación y dice son viviendas para uso turístico las viviendas cualquiera que sea su tipología que se ofrezcan o comercialicen con alojamiento por motivos turísticos o vacacionales

explotadora o gestora y comercializadas directamente por ella misma o indirectamente a terceros de forma reiterada o habitual y a cambio de contraprestación económica

de inmediata disponibilidad se incluyen de manera no exhaustiva ni limitativa los siguientes tipos de inmuebles las viviendas independientes

plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad

las construcciones prefabricadas o similares de carácter fijo se incluyen dentro de estas viviendas los apartamentos particulares los llamados estudios los pisos las denominadas villas o los chalets y a reglón de esto

en el mismo artículo tenemos esta autorización y la exclusión esto es garantía jurídica seguramente

esto es una indefensión para el propietario de una vivienda en el ámbito rural y es aquí donde esta proposición quiere incluir un párrafo como le decía que dice

excluida excluida por ley en los caseríos integrados en una explotación agraria o ganadera

de arquitectura tradicional característica de la zona que se encuentren ubicados

queda excluida en las viviendas radicadas en núcleos rurales

para el alojamiento en habitaciones de viviendas particulares para uso turístico en ningún lugar de la proposición de ley ni en la ley que pretenden modificar

de lo que se entiende por núcleo rural arquitectura tradicional característica de la zona

hablamos del goierri hablamos de la llanada hablamos de la montaña hablamos de rioja alavesa

cada una tiene su arquitectura tradicional muy diferenciada además de qué hablan en esta definición o indefinición

y ya para nota qué es un municipio o entidad de población de carácter rural no el municipio la población de carácter rural cuáles son

como le decía no al municipio o a la entidad de carácter rural es el ceño fruncido es la txapela tres roscas es la mantilla el delantal que jueguen al mus

me lo pueden definir cómo es el poblador con carácter rural

y si es rural tienen menor igual o mayor grado que la población de los municipios de la montaña cuál es el grado de ruralidad dónde lo definen oiga y los que somos mixtos que vivimos en el urbano y en el rural qué grado de ruralidad tenemos

la proposición de ley maneja como conceptos equivalentes

términos como ámbito rural medio rural territorio rural área rural núcleo rural y hasta como les he dicho el carácter rural el redactor demuestra

de tal modo que quiere acapararlo todo hasta el carácter oiga no le interesa definir le interesa acaparar porque siente que le pertenece y ahí es donde ustedes inciden lo que es suyo ustedes definen ustedes incluyen excluyen ustedes hacen registros

cerrar la sociedad el txoko no se pueden hacer espectáculos en los centros es prohibir es excluir es hace su registro es hacer su modelo de sociedad

la ley de veintiocho de julio de turismo contempló y reguló por vez primera el alojamiento tanto en vivienda de uso turístico como en habitaciones de viviendas particulares de

y tal como se expresa en la exposición de motivos son nuevas formas de alojamiento que por su innegable naturaleza de alojamiento turístico hace indispensable incluirlas en la ley la vigente ley no incluye estas nuevas formas de alojamiento en la categoría de establecimientos de alojamientos es decir

las casas rurales que constituyen una categoría diferente y suponen el ejercicio de una actividad empresarial cuyo régimen de tributación

económica empresarial o profesional en el régimen de estimación que proceda lo harán pero la prestación del servicio de alojamiento de una vivienda de uso turístico es decir el simple arrendamiento temporal por días semanas o meses

a cambio de una contraprestación económica en condiciones de inmediata disponibilidad a diferencia

de alojamiento no constituye esta actividad no es una actividad profesional o empresarial sino particular de su propietario y su régimen de tributación en el irpf es el de rendimientos del capital inmobiliario por lo tanto

aspectos totalmente diferenciados hay que decir que este asunto ya tuvo su debate a la hora de aprobar el decreto diez barra dos mil dieciocho al que se hacía referencia la ponente

las barreras ya se intentó excluir con el mismo texto que ponen ustedes en esos dos artículos para este tipo de alojamientos no profesionales para las viviendas de uso turístico y para las habitaciones de viviendas particulares para uso turístico

la autoridad vasca de la competencia concluyó que debía eliminarse restricción no necesaria ni proporcional modificando el decreto en cuestión suprimiendo la disposición afectada o bien como les decía modificando el decreto ciento noventa y nueve barra dos mil trece incluyendo

que las demás figuras alojativas y decía más la autoridad vasca de la competencia decía más independientemente del pleno reconocimiento legal de las viviendas de uso turístico y habitaciones de viviendas particulares para uso turístico situada en los núcleos rurales o en zonas clasificadas como suelo no urbanizable cualquier restricción

motivada proporcionada y favorecedora de la competencia una restricción consistente sin más en la prohibición en la exclusión por ley del alojamiento turístico en viviendas sitas en el medio rural además de ser contraria a la ley de turismo porque ese no es el espíritu de la ley de turismo

desproporcionada y contraria a la libre competencia

en igualdad de condiciones fruto de este informe

y se quedó redactada como usted ha dicho refiriéndose al artículo y qué le dijo el gobierno vasco

comisión nacional de mercados y competencia en respuesta a la solicitud referenciada le dijo y en cumplimiento de lo dispuesto en artículo veintiocho punto uno de la ley tres barra dos mil trece de cuatro de junio de creación de la comisión

el gobierno vasco le dijo que la respuesta era afirmativa que se podían incluir en el ámbito rural

y habitaciones para uso turístico de particulares por lo tanto aquí tiene una respuesta que usted no ha hecho mención a esto no ha hecho mención

de vivienda de uso turístico y la respuesta fue afirmativa

la proposición de ley insiste en prohibir en excluir en restringir en vetar la explotación les gusta mucho se han podemizado totalmente están

de estas nuevas políticas que han venido a excluirnos porque solo ellos son

en excluir en vetarnos en registrarnos ahí están por lo tanto yo lo quiere decir señoría que a juicio del grupo popular

pues no solo prohíbe la celebración entre particulares de un negocio jurídico expresamente a admitido y regulado en el código civil sino que es también contraria a derecho comunitario

esta proposición no pretende regular las viviendas de uso turístico en los núcleos rurales

si hay algo que choca tienen dos reglamentos tienen dos reglamentos para incluir en uno o en otro aquellas modificaciones pero lo que quieren es excluir por ley es una auténtica barbaridad ustedes conocen que ha habido una

de baleares sí que ha sido recurrida

ustedes les da igual no les importa ustedes a lo suyo a excluir a hacer registros de la sociedad vasca ahí están ustedes

no consideramos esta ley esta proposición de ley ni necesaria ni proporcional tal como ya

por lo tanto la exposición de motivos establece como uno de los motivos para excluir estas actividades en los núcleos rurales la protección

preservación del mundo rural la supervivencia del singular mundo rural así como el mantenimiento del sector primario de la arquitectura característica

que los que vienen los turistas que vienen a las casas rurales son de distinta condición que los que vienen viviendas de uso turístico son distintos unos vienen

hacen un censo previo o qué es esto es muy difícil no entendemos en qué afecta al medioambiente a la arquitectura tradicional característica al paisaje al mantenimiento del sector primario el hecho de que las personas que nos visitan o vacacionen

o agroturismos se alojen en viviendas particulares de uso turístico

pero por qué quieren hacer solo un modelo oiga y qué pasa el que quiere turismo de naturaleza

pero eso se hace en el ámbito rural también en zonas más aisladas por lo tanto no sé por qué excluir álava tiene

de álava especialmente al ámbito rural de álava por lo tanto cuando tenemos los peores datos de turismo en álava ustedes vienen a restringir qué pasa con el veinte por ciento de la población que estamos en el mundo rural que no hacemos actividad agrícola ni tenemos casa tradicional oiga es que no lo sé qué pasa nos vamos nos excluye nos hecha qué hacemos con todas esas edificaciones que hay en los pueblos

van a decir ustedes qué población va ahí ustedes hacen una selección y entonces colocan a la gente en esas casas digo yo no lo sé en realidad

ni con el medioambiente sino con que no vengan más que ya estamos bastantes muy típico por otra parte

lo dije aquí cuando hablamos del tema de la despoblación en el ámbito rural mucha culpa tiene

que no vengan más que bastantes estamos eso es un dicho muy típico del ámbito rural no favorecer frente a los propietarios de viviendas de uso turístico de alojamientos turísticos favorecer

como único modelo es que hay muchos modelos en el ámbito rural

rural es que tenemos que ofertar distintos modelos porque hay distintos tipos de clientes que quieren distintos tipos de experiencias en el turismo por lo tanto

cambiado totalmente los clientes turistas de percepción de sentimiento de ganas de participar en un ámbito rural pero no porque se ha ligado

si hoy nuestros pueblos tienen poquísima comunicación relación con la actividad agrícola y ganadera puede haber una vivienda o dos que se dedica a la actividad pero luego hay ochenta que no se dedican a la actividad por lo tanto que hacemos con esas viviendas

señorías ustedes lo que pretenden es establecer barreras no proporcionales ni necesarias

vasca de dos mil dieciséis y sobre todo conculca la legislación civil y las directivas comunitarias

en el comentario del gobierno para fijar su criterio favorable a esta proposición de ley

que la regulación ha de proteger la fijación en el ámbito rural de la población vinculada a su estructura socioeconómica y en consecuencia

oiga pero ustedes saben cuántas explotaciones agrarias hay en álava

que es como les digo el ochenta por ciento no están vinculadas la actividad agrícola y ganadera entonces cómo se puede decir

con el ochenta por ciento de esas viviendas que no están vinculadas a la actividad agrícola ganadera que no están

no son caseríos clásicos qué pasa qué hacemos cuando aquí en junio pedíamos medidas

a qué se referían todos apoyamos aquello a qué se referían como les decía excluir vetar

tenemos una gran responsabilidad excluir actividades económicas sin argumentos sólidos y contrastados

daños para el mundo irremediables el que se va si lo excluyo no va a volver efectivamente muy difícil volver entonces ustedes saben lo que están proponiendo

han hecho una evaluación socioeconómica del ámbito rural y lo que esto significa han hecho si estamos aquí hablando de la despoblación del gran problema que tenemos y ustedes vienen a excluir

cómo es posible que esto les parezca tan razonable cuando también la unión europea está haciendo una estrategia para

la población del ámbito rural entonces qué hacemos ustedes van contra toda ley europea estatal

qué informe medioambiental pueden acreditar con seriedad que la actividad

para el entorno que la de una casa rural yo quiero un informe medioambiental

que medio ambientalmente tenemos argumentos para prohibir esto oiga un informe porque a mí

que me diga cómo esto influye en el ámbito rural porque

no la excluye qué hacemos con las trescientos treinta viviendas o por ahí que están ya registradas en el ámbito rural para hacer este turismo las echamos las dejamos ilegales no porque ustedes no ponen una solución para eso

o sea que si hay trescientos treinta personas que están pensando que hay una oportunidad económica en el ámbito rural ustedes les dicen no fuera

ese lujo nos lo podemos permitir regulen en los reglamentos lo que consideren oportuno de acuerdo con el sector para que cumplan todos características muy similares entendiendo que unos son establecimientos turísticos y otros tienen bueno es un alojamiento de particulares eso es una diferencia

para eso no hace falta modificar la ley lo pueden hacer en los reglamentos pero es que no es voluntad de llegar a acuerdo señora corcuera como nos ha dicho usted aquí vía enmiendas no lo pueden hacer en los reglamentos y no lo quieren y tienen informes que les dicen que se puede hacer en los reglamentos y no los quieren usar tienen informes

excluir por ley porque son sectarios sectarios

único modelo yo controlo yo digo quién viene quién no viene quién hace actividad rural y quién no hace actividad turística en el ámbito rural eso es excluir pero de cuajo eso es fracturar la sociedad eso es clasificarnos si hablamos euskera o no hablamos euskera si somos de un txoko o somos de otro txoko

así ustedes paso a paso hormiguita a hormiguita nos van haciendo un registro de la sociedad

no estamos de acuerdo con esta proposición de ley tienen otros sistemas para regular esta

pero desde luego excluir una actividad no es legal eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko

gracias presidenta vamos a ver señora lópez de ocariz

hoy no disponen de una regulación específica como actividad en el ámbito rural porque la normativa vigente de esa normativa de la ley de turismo y de algún decreto se desprende esa intención de prever

a través de las modalidades de viviendas y habitaciones en viviendas particulares para uso turístico en eso estamos en una intención es lo que marca la ley a día de hoy

las viviendas de uso turístico y las habitaciones en viviendas particulares para uso turístico

hoy no están jugando en el ámbito de lo rural con las mismas reglas de juego

es que debe saberlo no están jugando con las mismas reglas de juego yo ya comprendo que a ustedes el tema de regular

les incomoda mucho pero a mí no me enseñe un informe de la autoridad vasca de la

que hoy le parece a usted que es el no va más en cuestión de informes cuando el mismo valor tenía en el año dos mil dieciséis ese informe de la autoridad vasca de la competencia que negaba que iba contra la ley de turismo que estábamos tramitando

de turismo del año dos mil dieciséis son informes no vinculantes informes que hablan desde el ámbito exclusivamente exclusivamente desde el ámbito de la competencia sin tener en cuenta más cuestiones o más asuntos que puedan desarrollar un determinado ámbito y le vuelvo a decir si lo hacemos a través de una regulación legal

que ese es el foco que da seguridad jurídica a una modificación el desarrollo reglamentario tiene unos límites tiene unos límites la regulación legal tiene otros y aquí estamos contemplando la directiva de servicios se lo vuelvo a decir está protegido el interés general

de hacer esta modificación legal por lo tanto no se trata de excluir no se trata de prohibir no se trata de no permitir no se trata de indefensión

de esta modificación de esta proposición exclusivamente para poder darle la posibilidad y el cauce de tramitarlo de tramitarlo a través de enmiendas

modificar esta proposición en aquellos ámbitos o cuestiones que le parezcan a usted de absoluto desbarre de la cuestión pero mire hay más

aquí no estamos prohibiendo distintos modelos

en el ámbito rural sobre alojamiento para nada queremos que convivan

pero para ello no vale que unos no estén regulados y otros sí no vale porque entonces estamos realmente

a los que están asumiendo todas y cada una de las cuestiones legales reguladas es que ese es el problema es que ese es el problema y le he dicho

y vamos a ir a intentar llegar como sea sí o sí a un acuerdo al más amplio de los posibles consensos evidentemente no estarán todos los conceptos a día de hoy evidentemente no estarán todas las definiciones que todos los grupos políticos queremos que estén en esta proposición pero podemos lograrlo

podemos lograrlo a través de enmiendas y podemos lograrlo a través de una negociación en ese debate para que tenga lugar una modificación de la ley de turismo

intereses que hoy en día son contrapuestos y son contrapuestos porque unos tienen regulación y otros no por eso son intereses contrapuestos que el camino está mucho más difícil para seguir manteniendo una actividad económica que otros que tienen tan solo una cuestión de la ley porque le remiten a un decreto del dos mil trece

les deja en la absoluta alegalidad no hay nada a lo que sujetarse por lo tanto la actividad es absolutamente

sin requisitos y eso no puede ser cuando unos en el ámbito rural tienen condicionantes tienen requisitos para acceder a ser un agroturismo o una casa rural

una vivienda de uso turístico no y es más debemos ser conscientes de que cuando uno hace una regulación legal no es para que dure dos días dos años se trata de que haya que mirar también el futuro

hoy somos más conscientes que nunca de cuáles han sido los problemas que han tenido las viviendas de uso turístico las habitaciones en viviendas de uso turístico en los núcleos urbanos en las zonas urbanas en las ciudades

de que ha habido muchos problemas que ha habido picaresca que ha habido viviendas no reguladas viviendas no inscritas a día de hoy todavía se están persiguiendo ese tipo

clandestinas por lo tanto hay que prever que es posible que es posible si no está regulado que haya también una masificación

porque hay que aprovechar donde no hay legalidad hay que aprovecharlo no hace mucho tuvimos un ejemplo con otra cuestión cuando no funciona no hay ley a la que sujetarse

yo respeto su posición yo desmanes y además

hay desmanes hay desmanes porque se aprovechan las circunstancias para establecer por ejemplo

en un problema o puede convertirse en un problema de esta índole y también hay que prever por eso tenemos cierta perspectiva también en el tiempo temporal no se trata de que algunos nos hayamos convertido en o nos hayamos podemizado oiga

hoy vengo de podemos y mañana vengo de nacionalista oiga yo soy no

lo que tengo muy a honra es ser socialista punto

yo soy socialista yo no soy ni de elkarrekin podemos ni del pnv soy del grupo socialistas vascos y lo llevo de verdad que a mucha honra y con mucho honor le decía

la ley evidentemente nos va a permitir

la proposición en el día de hoy nos va a permitir introducir una serie de medidas que permitan ajustes porque evidentemente hay que hacer ajustes en esos ajustes de esos intereses contrapuestos tenemos que lograr

realmente está hoy teniendo una vivienda de uso turístico o que realmente alquila una habitación para uso turístico ha hecho unas inversiones lógicamente no podemos forzar de ninguna de las maneras porque no es nuestra pretensión el hecho de llevarles a realmente obligarles a que formen parte de un agroturismo o de una casa rural

que en la tramitación pueda haber enmiendas que permitan esos ajustes de intereses esa coordinación

ni unos ni otros se sientan agraviados por una ley como es la ley de turismo

la ley de turismo está produciendo agravios seguramente no fue voluntad de nadie de los que estuvimos o intervenimos en la ley de turismo en el fomentar esos agravios seguramente no fue voluntad de nadie de los que

generar esos agravios no lo fueron pero los hubo pero los hubo y como los hubo tenemos que intentar remediar esta situación yo vuelvo a decirle

que nuestro grupo porque se ha reunido con las partes afectadas se ha reunido con todos ellos y nosotros lo hicimos particularmente con cada uno de ellos

queremos que todos se sientan concernidos por la ley en el buen sentido que todos puedan practicar una actividad económica en el medio rural pero sujetos a las mismas reglas y para eso estamos abiertos a negociar

y hemos pretendido salvaguardar los intereses de todos también de esas personas que han hecho inversiones y que hoy pueden verse afectados por una ley entendemos que hay margen para cambiar para modificar esa ley y yo lo que sí le pediría es contar con usted

usted pudiera hacer las aportaciones que considerara oportunas

me sorprende me dice que ustedes no pretenden excluir oiga le leo el texto otra vez

excluida los caseríos tata tata tata queda excluida se nota que es socialista

aunque efectivamente tienen giros qué me está diciendo por favor

excluir y lo han hecho a conciencia y a sabiendas de lo que hacían

no contempla esto es precisamente porque ustedes no quisieron

trampa una disposición trampa porque era una disposición tramposa ustedes lo saben qué estaba regulando primero esto mismo en aquella disposición cuando la autoridad vasca de competencia les dijo que no

una disposición tramposa para luego ir a la ley y excluir por ley que hay que tener cuajo al mes

puedo evidenciar que tiene un punto de socialista efectivamente

mire vamos a modificar toda la exposición de motivos porque es que es lamentable cada vez que la leo

porque yo he nacido me he criado vivo de la y he vivido y soy lo que soy por la agricultura por el mundo rural y que me vengan a decir

establecer barreras de protección del mundo frente a la irrupción de personas

en formas totalmente desconectadas del objetivo principal que no es otro que tratar de facilitar la supervivencia del mundo rural vinculado a las características básicas que lo singularizan

esto parece alguien que ha venido de marte de verdad pero cómo se puede escribir esto la actividad económica vinculada

asentamiento humano de la arquitectura característica del paisaje y medio rural de verdad

pretendan poner en marcha por ejemplo un alojamiento turístico les vamos a poner barreras pero por qué que estemos los que estamos que no somos cuatro y mañana seremos tres y pasados dos a eso van o qué

nos van a poblar no o sea aniquilo lo que hay los echo a todos fuera y luego ustedes traen los pobladores les estoy viendo sí

nada se dice en su iniciativa de quienes ya están desarrollando como le decía las actividades en los núcleos rurales ha habido algún elemento

todo eso que dice en la justificación lo pueden demostrar porque ya tenemos gente haciendo esta actividad en el medio rural verdad que se ha destruido el medio ambiente el paisaje los caseríos han cambiado el carácter de la población rural se ha transformado

son opciones y es que no son iguales no pueden jugar con las mismas reglas de juego porque no son iguales porque

de la inversión que vaya a hacer eso también lo vamos a poner a las viviendas de uso turístico

de manera diferente que ustedes tuvieron la posibilidad de hacerlo en el

lo podían hacer en el de trece modificándolo tampoco quieren por ley y señorías de verdad

les voy a leer más de la exposición de motivos la situación es muy distinta en el caso de las viviendas particulares para

de vivienda particular para uso turístico en el ámbito rural supondría abrir una vía de afluencia de turistas a las áreas rurales desconectados de los objetivos de la preservación de sus características distintivas oiga que vienen los astronautas ya pero

dice que si vamos a hacer enmiendas de la a a la zeta le vamos a cambiar esta exposición de motivos desde luego

que dada la escasa dimensión de la sociedad rural efectivamente que estamos pocos puede ser una fuente de riesgo de rotura del frágil equilibrio sobre el que se asienta

exceptuar en el ámbito rural las dos modalidades

estamos pocos que no vengan más lo que le digo que ya lo vamos a poblar verdad de esos que tienen ustedes características como le decía pues que hagan lanzamiento de moñiga que jueguen al mus que lleven

eso no eso es la población adecuada del entorno rural que ustedes consideran señorías

desde elkarrekin podemos hemos manifestado siempre la importancia del turismo rural en euskadi hemos hablado muchas veces

un turismo que dé protagonismo a la riqueza de la naturaleza de nuestra comunidad y a sus diferentes posibilidades de ocio que ponga en el centro nuestros paisajes y parajes

también lo hagan a las zonas rurales y que las ofertas de ocio y las ofertas culturales se incrementen y el turismo sea también importante en la economía de los municipios más pequeños es una evidencia compartida que la actividad turística en general y el turismo rural en particular

y desde las instituciones tenemos que adaptarnos y actualizar las diferentes normativas y leyes y los nuevos retos y realidades

muchas han sido las casas y caseríos convertidos en alojamientos turísticos ayudando muchas veces a preservar el patrimonio arquitectónico rural

espacios que han concentrado tradiciones y saberes en sus muros y campos y que debido a su gran tamaño y ante la falta de relevo generacional en su uso para la agricultura se abandonan y se les da un uso turístico en los últimos tiempos conscientes de que nos encontramos frente a una crisis

hay que buscar soluciones que estén a la altura el ecoturismo nos ofrece soluciones que van un poco más allá buscando un turismo responsable con el medio ambiente y la sociedad local

trece barra dos mil dieciséis del veintiocho de julio que hoy nos traen los grupos que sostienen al gobierno vemos importante y compartimos la necesidad de regular de forma específica las viviendas y habitaciones de viviendas particulares en entornos rurales compartimos parte del diagnóstico que se realiza en la exposición de motivos del texto

estamos de acuerdo en acotar el mercado de los alojamientos turísticos rurales para que no se produzca una situación de desprotección una burbuja similar a la que se ha producido

urbanas y que cualquier propietario o propietaria pueda alquilar y explotar su alojamiento sin control y lo que es peor

las que monopolicen el sector ya conocemos cuáles son las consecuencias negativas de estas prácticas

pero para nuestro grupo parlamentario el desarrollo normativo hay que realizarlo contando con todos los agentes del sector desde la coordinación interinstitucional y la cooperación de los diferentes

o se ven afectadas por la actividad en los alojamientos y viviendas en el entorno rural y para ello antes de desarrollar esta modificación había que haberse sentado hablar

las asociaciones de titulares de viviendas de uso turístico y habitaciones particulares para uso turístico para que esta modificación defienda los intereses de todas las personas propietarias

pero sobre todo para asegurar que los cambios y modificaciones tienen como objetivo ayudar a fomentar un modelo de explotación respetuoso y sostenible

además de que sirvan para incentivar las economías locales cada vez hay más iniciativas tanto privadas como públicas que quieren formar parte de este cambio por una parte evitar la despoblación rural y la pérdida de patrimonio y por otro lado

para todos sus habitantes por eso nos hemos abstenido porque aunque entendemos que es necesaria la regulación también creemos que hace falta un debate más participado y completo de la situación

en alojamientos y viviendas rurales en euskadi pero contrastando y consensuando las medidas a poner en práctica para no crear más problemas de los que se pretende resolver

con este espíritu constructivo y conciliador en el proceso que ahora se abre trabajaremos para mejorar el texto que nos han traído hoy mila esker eskerrik asko garcía andrea

zuzentzeko aukera izango dugu antes la señora lópez de ocariz y no voy a entrar a rebatirla porque no está permitido en este turno caricaturizaba

de esta ley y lo hacía con cierto gracejo y también con cierta razón luego ha entrado en una deriva ultraliberal que evidentemente no comparto me resulta curioso

sea abrir las puertas al estalinismo y sin embargo decretazos que cercenan las libertades civiles en el ámbito digital o que pongan cámaras de vídeo en la estación de autobuses de bilbao para identificación facial el sumun del liberalismo y de las libertades públicas pero bueno

tenemos aquí un debate que quizás para muchas de las personas que están escuchándolo en esta cámara sea un tanto oscuro y no se pueda entender cuál es el fondo de la cuestión pero si lo planteo en otros términos seguro que lo vamos a captar enseguida esto es un poco contra el uber el taxi tiene una regulación estricta paga unas licencias

obligaciones fiscales laborales etcétera etcétera y uber viene a cubrir un espacio similar pero con una autopista de amplitud y de margen jurídico que los taxis no tienen por tanto se constituye en una

en cierto modo desleal entendemos que se ha constituido un modelo de éxito en el turismo rural vasco que por un lado en el caso de los agroturismos

en locales o en casa donde se realiza una actividad agraria

pero ofrece a las personas que desarrollan ese tipo de actividades la posibilidad de complementar sus ingresos mediante la figura de alojamiento turístico y también existen casas rurales

sin desarrollar una actividad agro ganadera se puede hacer una oferta

muy tasada muy regulada que como decía ha hecho que este país en su oferta de turismo rural sea percibido como una oferta atractiva como tal porque está bien regulado lo que se tiene que ofertar en este espacio y lo que no queremos es que lo que está funcionando y está funcionando bien y está ayudando al desarrollo del medio rural ahora quede

de sobrexplotación en el ámbito turístico rural que den al traste con este modelo esandakoa akatsak zuzentzeko aukerak badaude

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi sin enfadarme sin subir un tono que no merece el asunto

sin partido popularizarnos hemos votado que sí obviamente porque entendemos que esta ley que nosotros hemos co propuesto necesita tramitarse porque tras escuchar a gente y organizaciones sectoriales hemos visualizado

no terminamos de profundizar en un tema específico como el del mundo rural que lo dejaba de alguna manera en cierta legalidad que nos obliga a abordarlo

lo que hemos hecho hoy es admitir a trámite que se haga esa ley

y lo que no se puede hacer es poner a parir un proyecto de ley porque no me gusta

hay que abordar el tema también es cierto que el proyecto de ley tal como se ha presentado así de entrada parece que pudiera generar

no es un problema pues ya lo hemos comentado más de una vez entre los grupos vía enmiendas estoy seguro de que lo vamos a arreglar ahora bien es un proyecto que independientemente de futuros ajustes de carácter jurídico surge porque además de como ya he dicho faltan por regular algunos aspectos alrededor de la materia se generan dudas y controversias más allá de las jurídicas digamos más bien de filosofía lo que en sí mismo sin ser ni bueno ni malo obliga a una reflexión y un debate para que este parlamento y los grupos políticos que lo conformamos

lo que yo creo que no solo es posible es que lo vamos a lograr voy a hacerme sin más cuatro preguntas se puede hacer

en materia de pisos y habitaciones turísticas tiene sentido tiene lógica si se nos llena la boca de que el medio rural languidece y el turismo

al mundo rural cómo debemos organizar el turismo en ese ámbito para promover de verdad desarrollos económicos es el medio rural el guardián de las esencias de la cultura del paisaje y de la filosofía de un país

quien acepta unas reglas y unas normas de la administración para dotarse de servicios cualificados tiene que competir de tú a tú con quién no lo hace

son cuatro preguntas que no son retóricas son preguntas que me surgen cuando reflexiono sobre este tema

se trata de que contestemos a lo largo de la ponencia del debate de la ley pactemos las respuestas

este texto de borrador de proyecto de ley por eso hemos entendido que se debe tramitar para que la información

los diferentes agentes y personas que operan en este sector nos ilustren en la faena y para que todos los grupos seamos capaces y en eso nos vamos a empeñar de alcanzar acuerdos de mínimos por eso hemos votado que sí porque aunque es una ley corta

conflictos y problemas que no podemos ni debemos de olvidar que tenemos que contemplar y porque estoy seguro

tienen ganas casi todos alguno parece que no tienen ganas de abordarlos para llegar a acuerdos que permitan que el medio rural continúe desarrollándose justa

contara en un par de minutos y de manera que se entendiera

con la ley de sostenibilidad energética con su desarrollo y sobre todo con la ausencia en el proyecto de presupuestos

de cien millónes destinada a que los ayuntamientos desarrollen la ley

fabuloso un timo de fábula y en realidad contaría la fábula del escorpión y la rana

en la fábula decía que el escorpión quería pasar a otra orilla allí donde había un río no entiendo que a la orilla de la sostenibilidad no el escorpión no saben nadar entonces el escorpión

hay que llegar hay que pasar el río de la sostenibilidad hay que llegar a la sostenibilidad entonces la rana que conoce al escorpión le dice ya pero tú picas tenemos un problema el escorpión le dice no no pasa nada yo pico pero como yo voy a ir montado

nos hundimos nos hundimos los dos en este barco estamos todos en este barco estamos todos entonces después de algunas dudas pues al final

y a nada que se meten el río el escorpión

el escorpión pica evidentemente se empiezan a hundir y le dice la rana pero qué estás haciendo no habíamos quedado que nos íbamos a hundir los dos

pues ya lo siento porque esta es mi naturaleza básicamente

batzordeak oficina de control económico decía decía en un informe muy contundente cuando se le presentó la ley

que en conjunto el expediente no ofrece una visión de conjunto suficientemente fundamentada ni una estimación de su repercusión en los presupuestos de la administración pública ni las fuentes y los modos de financiación así como una elemental evaluación del coste que pueda derivarse de su aplicación para otras administraciones públicas los particulares y la economía general han de subsanarse

la memoria económica que debe completar el expediente de este anteproyecto no ha cuantificado el impacto económico que estas obligaciones tendrán en las haciendas municipales

porque solo desde esa cuantificación en el texto legal que propone nuevas obligaciones a las competencias municipales también debe recoger la financiación de no hacerse así la ley no cumple el ordenamiento jurídico local vigente y es susceptible de impugnación gero

y ahí en el artículo diecisiete punto tres en esa ley que se aprobó en un acuerdo con nosotros precisamente se decía que las leyes y normas forales que atribuían competencias propias a los municipios así como los desarrollos reglamentarios de aquellas leyes sectoriales

derivadas de competencias atribuidas como propias deberán recoger en un anexo específico la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia

y ese día se aprobó la ley y hubo una cierta satisfacción hubo una cierta celebración no el señor grajales dijo aquí que era uno de esos días que se hace grande

podemos dijo que se aprobaba una ley efectiva ambiciosa vinculante y aplicable

la parte aplicable y leo el diario de sesiones decía porque tiene un instrumento de financiación y en eso tenemos que darle las gracias también a las aportaciones que han tenido otros grupos especialmente euskal herria bildu tiene

de cien millónes de euros es una ley aplicable porque tiene dinero para aplicarse por detrás

lo que dijo podemos el señor el señor becerra así que la ley quedó redactada como se ha dicho varias veces aquí que en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior con el fin de facilitar las inversiones se constituirá una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales y dice la ley que la herramienta financiera se constituirá con una cantidad mínima de cien millónes para facilitar las inversiones y tal y tal hori martxoan izan zen udan jaurlaritzak lehendakaria buru zuela

cuando llegaron los presupuestos el mismo día que llegaron pues yo lo primero primerísimo

estaban reflejados esos cien millónes de euros repasé todo el dinero el departamento de la señora tapia

no lo encontré y dije uy se me estará escapando algo yo no sé si se acuerdan varios de los parlamentarios de mi grupo

será que soy yo que soy torpe mirando los presupuestos que puede ser y digo no encuentro

el fondo la herramienta por ningún lado los cien millónes tanto

se ha comprometido contigo y ha firmado una ley en la que aparece expresamente recogido que va a estar ese dinero

vuelvo a mirar nada vuelve a mirar nada

y digo eh qué pasa con esto qué pasa con esto me encuentro con un

de libro y entonces décimos bueno esto no puede ser esto hay que preguntar empezamos a preguntar respuesta de azpiazu a

está aún por determinar la naturaleza del instrumento financiero pero muy sea un instrumento mixto subvencional y financiero no descartándose la participación del instituto vasco de finanzas para su gestión yo lo vi verde

están en el instituto vasco de finanzas que tiene bastante recursos

recursos hay y suficientes pero tenemos que dotarnos de un instrumento que permita a los ayuntamientos para poder hacer inversiones sin que sean consideradas como endeudamiento

vamos a hacer una interpelación en la interpelación la versión ha cambiado ya la versión ha cambiado ya porque había recursos suficientes pero ahora ya no está tan claro

textual esos cien millónes a los que hacíamos referencia que no son en un ejercicio sino que son en varios ejercicios y también nos dice en todo caso

eudel advirtió desde el año dos mil dieciséis y han tenido tres años para hablar con eudel estas enmiendas llevan más de año y medio dando vueltas y la ley lleva aprobada desde febrero de este año todavía no sabemos si va en el instituto vasco de finanzas todavía no sabemos en cuántos años va a ser todavía no sabemos nada

las labores de vigilancia de inspección de control del cumplimiento de las obligaciones de la ley también son el objetivo que nos preocupa eso sí

consignado eso sí del resto ni una palabra ahí ya es cuando veo que se está cerrando el círculo

y digo efectivamente esto ha sido un timo y me acuerdo y me acuerdo y lo he traído de la mejor tesis que yo he llegado a leer acerca de la crisis económica que es una tesis realmente muy breve pero yo creo que lo dice todo

hemos sido engañados evidentemente no está no es una tesis que no

cum laude pero desde luego que es una tesis muy acertada

gracias presidenta y buenos días a todos bueno yo creo que no debiéramos de hablar en este tema ni de timos

ni de nada de esto usted señor otero tuvo un protagonismo principal en la negociación de la ley usted negoció con el gobierno y usted sabía qué negociaba

cuando el gobierno o los partidos que sustentamos al gobierno presentamos una enmienda que no pone claramente los cien millónes no lo hace porque cuando uno lee la literalidad de la disposición adicional quinta ya habla de esos cien millónes no quiere decir que por no ponerlo renunciemos a la cantidad

y lo sabe usted lo sabe el gobierno y lo sabemos todos los parlamentarios que aquel día votamos a favor en este mismo pleno creo que estos presupuestos usted el proyecto de presupuestos que se ha presentado y que ya veremos qué sucede con ellos hace muchas cosas a favor del clima

en el que aparecen partidas presupuestarias diferentes que ya veremos

en qué acaba la negociación con quién se negocia y qué vota cada uno por tanto la enmienda del gobierno viene a decir que se cumplirá lo que el gobierno

cómo y de qué manera se va a hacer creo que en este debate debiéramos de huir de volver a hablar de qué era lo importante cómo llegó la ley cómo no llegó la ley lo importante es que aquel día aprobamos ese proyecto de ley

y por lo tanto creo que con eso ya queda claro cuál es el compromiso de todos y cuál era la preocupación de todos creo que nadie cuestiona lo que en aquel día

es el foco principal de la iniciativa que

hoy por tanto como digo hace unos meses ya debatimos el contenido de la ley durante mucho tiempo se debatió a puerta cerrada cuáles eran los matices que cada grupo parlamentario proponía y como digo usted sí tuvo un protagonismo principal es cierto que usted se dirigió a mí preguntando por aquello y mis compañeros del grupo parlamentario también pueden reconocerle que hemos hablado en muchas ocasiones dónde están los cien millónes de otero

porque es verdad que usted estaba preocupado porque no encontraba aquello que entendía que había negociado y en mi grupo parlamentario yo también

porque reconozco que no soy una experta en la materia soy de letras puras puras y me cuesta entender los presupuestos dónde estaba aquello esa herramienta financiera

en los presupuestos por tanto quiero decir que fue una preocupación compartida la suya la mía y entiendo

porque entendíamos que era lo suficientemente importante esa partida y tenía una entidad lo suficientemente bueno pues determinante para poder llevar a cabo aquello de lo que

en aquel momento y entonces yo le voy a poner un ejemplo para que vea que no me evado del tema y que creo que ahí está la respuesta de por qué no aparece de una forma textual en ese proyecto presupuestario hay instrumentos que son complejos a la hora de establecerlos en una ley de presupuestos

casi tres hablando de un fondo público privado para impulsar empresas tractoras en euskadi como digo fue aprobado

pero han hecho falta más de dos años para articular en el instituto vasco de finanzas

europea sobre ayuda a las instituciones o entidades lo que usted nos plantea hoy y que ya aparece en lo que ya es una ley de sostenibilidad energética estamos hablando de un instrumento financiero que requiere de un procedimiento mucho más complejo que aparezca una partida presupuestaria pues con el nombre claro tal y como usted pide por tanto el gobierno

en la negociación de la propia ley el gobierno vasco está trabajando internamente para articular la herramienta de la que habla la disposición adicional quinta con esos cien millónes

entiendo que el gobierno lo hará lo antes posible y su intención desde luego es hacerlo en este ejercicio presupuestario no olvidemos que no hace un año que aprobamos esta ley y que desde luego las leyes como usted sabe son de obligado cumplimiento por tanto

porque hace falta un procedimiento concreto porque no siempre se pueden hacer las cosas como algunos creemos cuando aprobamos determinadas cosas y porque nadie cuestiona la necesidad de seguir implementando medidas para ahondar en lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia aquel proyecto de ley supuso una ampliación en los compromisos del gobierno vasco para poder ahondar en lo que tiene que ver con la energía y como digo creo que fue lo suficientemente respaldado

por tanto creo que es más una cuestión de procedimiento como le digo el gobierno está trabajando internamente porque no solo depende

y no tengo la menor duda que desde luego usted podrá encontrar ese fondo esa herramienta financiera que pactó con el gobierno y que además aparece en la ley de forma literal y por tanto había usted nos ha hablado de la fábula de la rana y el escorpión eso al final

que se llama el gusanillo desconfiado le invito a que la lea porque es que usted partía en la negociación de una desconfianza hacia el gobierno

era lo que tenía que hacer para apuntalar lo que tiene que ver con la política energética pero no caiga en la desconfianza no vaya a ser que al final acabe siendo usted perjudicado y que se quede más en aquella forma o en aquella

que fue que esta cámara parlamentaria aprobó por casi mayoría total con cuatro de los cinco grupos

en aquella respuesta es que esta parlamentaria se preocupó de buscar dónde estaban y creo que le he podido dar la respuesta nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

bidezkoa ez delako yo no sé en qué momento me he equivocado pero la enmienda dice el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta de la ley cuatro barra diecinueve de veintiuno de febrero de sostenibilidad energética de la comunidad autónoma vasca

dos mil veinte a constituir una herramienta financiera y esto debe ser

pues será que se me ha olvidado leer entre otras muchas cosas que no sé últimamente o que se me olvidan será que leer no sé voy a la ley y la ley dice en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley

exactamente lo mismo durante el ejercicio presupuestario de dos mil

pero oiga usted que conoce la ley tan bien como yo estará de acuerdo

se pongan a pedir ayudas o subvenciones en su caso para llevar a cabo lo dispuesto en la ley

planes de movilidad igual tienen que empezar a hacer auditorías y luego vendrá

a todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de esta comunidad autónoma diciéndoles que estén tranquilos que el gobierno va a cumplir con la ley en el plazo dentro del ejercicio presupuestario de dos mil veinte en la cantidad establecida un mínimo de cien millónes de euros y que no va a haber

ni uno solo que pudiendo entrar en los supuestos que la ley indica se vaya a quedar

sin recibir lo que le corresponde ninguno por lo tanto tranquilidad

ni trampa ni cartón aquí usted ha empezado con una fábula pues vamos a terminar todos con la fábula aquí yo no sé si hay escorpiones

a mí esto lo que me recuerda es aquella fábula de la liebre que corría mucho sabe usted y de la tortuga que iba

y que era la que terminaba llegando a la meta ganando la carrera

desde luego que aquí limpios somos porque limpiamos todos pero no será por aquí la cuestión es el baño de realidad que nos tenemos que dar a día con limitaciones políticas con limitaciones sociales con limitaciones económicas con limitaciones presupuestarias técnicas tecnológicas y las cosas en esta tribuna se plantean muy fácil pero luego el día a día es mucho más complicada cumplir y este departamento si no me equivoco

toda la normativa posterior de la ley como son por lo menos dos decretos que la regulan tiene que

no han tenido tiempo de hablar con eudel bueno primero se tendrán que poner de acuerdo en cómo se lleva a cabo

y el departamento de hacienda que es el que tiene en este momento el dinero porque el dinero está aunque usted no lo vea el dinero está y después pues a mí me parece lógico y me parece de justicia que se hable con los mayores implicados que no hagamos un pan como unas tortas que no creemos una herramienta financiera que termine consolidando deuda a los ayuntamientos

a mí me parece que las cosas hay que hacerlas bien aunque tarden un poquito más y en este caso además como les digo teniendo en cuenta exactamente

en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley que si no me equivoco va del uno de enero al treinta y uno de diciembre

que la fecha de puesta en vigor de la medida sea bastante más cerca el uno de enero

estarían cumpliendo con lo dispuesto en la ley y termino

si luego nos tenemos que hundir juntos ya nos hundiremos juntos no tenga usted problema pero no quieran ustedes correr demasiado porque luego las cosas sale mal y además

el gobierno hasta donde yo sé en este momento llega tarde a autoenmendarse los presupuestos

a ustedes a ustedes a los que les corresponde hacerlo si creen que eso de alguna manera tiene que estar ahí reflejado

pero ahí tienen ustedes su oportunidad yo les lanzo el guante y ya veremos de aquí hasta el día de los inocentes qué es lo que tenemos eskerrik asko

gracias señora presidenta señor otero efectivamente

pero para encontrar eso se tiene que remontar usted al siglo pasado por lo menos efectivamente como ya se ha dicho tiene

la desvinculación gradual de la producción de la energía fósil la promoción de la movilidad sostenible la reducción de la factura energética de las administraciones públicas

y la energía objetivos

al papel ejemplarizante de la administración de las administraciones públicas vascas bueno ya usted ha puesto de manifiesto con su iniciativa que de ejemplarizante nada fallamos en el principio por lo tanto aquí ya estamos incumpliendo la ley y para ello

energética pues es preciso la puesta en marcha de las medidas obligatorias o establecidas en esta ley y de la normativa a desarrollar

deben contar con un estudio de sostenibilidad energética correspondiente y que incluirán estos estudios

específicamente saber dónde somos sostenibles y dónde fallamos

desde la autonómica a la municipal y sus empresas del sector público creación de las comisiones de sostenibilidad que son las responsables de hacer los inventarios en sus edificios del parque móvil de las instalaciones de alumbrado público pasando por el inventario de consumos y su control en un año

de la aprobación todos los edificios e instalaciones de las administraciones públicas deben tener instalados los contadores de energía eléctrica

el control del consumo de energía por edificio que incluirá los consumos de todas las energías utilizadas y su coste económico que se realizará una vez al año con base mensual todas las administraciones deberán diseñar sus propios planes de actuación energética con carácter plurianual pero lo tienen que hacer en el primer año

que contengan evaluación y diagnóstico de su situación y

autonómica la universidad las administraciones territoriales los municipios aprobados sus planes en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley

para ello se va a contar con la guía de instrucciones que desde la dirección de energía debe estar elaborada que no sé si está la utilización de energías renovables la renovación de instalaciones los equipos flotas de vehículos los planes de movilidad para todos los ayuntamientos

en el primer año todo esto hay que hacerlo en el primer año lo dice la ley

y estar inscrito en el registro correspondiente a partir del año dos mil veinte el cien por ciento de los vehículos que se adquieran el uno de enero a partir del uno de enero

son algo más caros verdad todo esto como les decía en el primer año

un aumento considerable de recursos técnicos de recursos humanos y económicos y por ello efectivamente esta ley

que el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior que es el que tenemos en este momento trabajando encima de nuestras mesas verdad

pues el gobierno vasco con el fin de facilitar las inversiones a realizar en su aplicación además de ser ejemplarizante pues se compromete a poner una partida pero también ejemplarizante que lo dice entre los objetivos verdad y

una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales que esa herramienta financiera se constituirá con una cantidad mínima de cien millónes de euros mínima

que la herramienta se irá reconstituyendo por medio del retorno de las ayudas recibidas

que reciban financiación previamente en función de los retornos derivados del ahorro energético lo que podríamos llamar un fondo reintegrable que hay que elaborarlo hay que hacer el texto hay que ver cuáles van a ser las condiciones los requisitos de acceso los procedimientos de abono de reembolso los anticipos

es elaborar el texto para que entre a funcionar el uno de enero no lo han hecho eso no cuesta dinero no tiene que estar en los presupuestos lo tienen que tener elaborado

y qué han hecho durante este año pues nada no han hecho absolutamente nada entonces de ejemplarizante nada obligaciones para los ayuntamientos porque esta legislatura cada normativa que traen cada ley que se aprueba aquí que

es cargar responsabilidades sobre los ayuntamientos

económicos humanos de técnicos y por lo tanto señorías es que es una desproporción el otro día trajeron ustedes a comparecer a una alcaldesa de su partido

que tienen los ayuntamientos pero es que además aquí les cargan otra vez y además dicen no te voy a poner una ayuda pero no la ejecutan oiga de verdad es que es tremendo

pero vamos que no gasta ni uno en lo que corresponde lo dedica a otras cosas pero aquí

inmediata los pone en el otro y ahí está no no ha hecho no ha desarrollado el fondo reintegrable por lo tanto no tiene posibilidad de aplicarlo

y no está y creo que se puede disponer de nada en este momento porque si no está regulado pues desde luego para el uno de enero no va a estar y

para el uno de enero del año dos mil veintiuno probablemente tampoco se van a inventar otra historia pero no van a cumplir la ley lo tengo

en este proyecto de ley de presupuestos en este no vale que usted me diga que habrá que tenga paciencia que va a estar todo es más a más les escucho

akordioa ez betetzearekin usted me dice que su enmienda exactamente lo mismo que la ley sí claro si les recortas la parte en la que dice que

porque no están en camino se le olvida la dotación y usted todavía

tiene la habilidad de pasarles la pelota a los ayuntamientos diciendo es que tienen que hacer ellos los planes de movilidad tienen que hacer

usted haga lo que tiene hacer usted que es poner los cien millónes de euros encima de la mesa y después los ayuntamientos el gobierno el gobierno el gobierno así que

aquí alguien está mintiendo no sé no sé quién es de todos

alguien está mintiendo porque usted dice que se va a cumplir la ley y en la cantidad de cien millónes establecida bai

tendrá a disposición cuando se refiere a tendrá a disposición los ehun millónes de euros

instituto vasco de finanzas programa de créditos a empresas cien millónes de euros

van a finkatuz en esta consignación presupuestaria o por lo menos así aparece

los cien millónes que dice usted que va a poner para el desarrollo de la ley de sostenibilidad energética cuando cien millónes están comprometidos presupuestariamente para el fondo finkatuz le quedan dos según esta cuenta le quedan dos y esa es una cuenta muy sencilla así que

que sepamos todos que la proporción de inversión por cada año en las administraciones locales sea de unos sesenta millónes de euros y luego resulta que en la negociación presupuestaria azpiazu nos dice que pero que eso ya hay diecisiete millónes en el eve suficiente para lo que hay cómo suficiente lo que nos están diciendo es que en ningún caso tienen pensado el dinero el gobierno se comprometió decía la señora rojo sí a poner los cien millónes a eso se comprometió no solo a crear el fondo dice usted

aquí está el dinero para finkatuz han tenido veintiuno meses desde que el señor becerra había acordado ya en febrero de dos mil dieciocho porque la ley se aprobó

ya estaba acordada la enmienda que decía que había que crear la herramienta el instrumento financiero veintiuno meses desde que se acordó aquello

por favor es que no ha habido voluntad es que no hay intención de poner ese dinero

fábula de animales que van saliendo ustedes tienen un problema que es de tragarse sapos claro claro

están diciendo que son buenos unos presupuestos favorables al clima

están incluidas y hablaremos mañana de ello el tav el

un poco de todo y ustedes se van a tener que un sapo detrás de otro y esta actitud me ha recordado y voy a terminar con esto

es duro lo que voy a decir pero yo creo que tengo que decírselo por honestidad política hay una escena hay una escena que ya es legendaria de la serie the wire

de lo que uno quisiera hacer y lo que hace hay una escena

le dice lo que es la esencia de la política la esencia política gobernar le dice

beberse una taza de mierda tras otra y yo no sé cuántas tazas

ustedes sabrán los motivos y lo que quieren solo le pido un favor solo le pido un favor que le llame por su nombre a las cosas

le den la carta de naturaleza verde a estos presupuestos
los presupuestos del clima porque desde la ecología política duele y duele mucho eskerrik asko otero jauna becerra jauna

señor otero usted qué parte de nuestra enmienda no ha entendido de lo que hemos presentado qué parte no ha entendido para hacer este discurso aquí

tiene toda la razón en pedir los cien millónes de euros y en pedirlos en estos presupuestos y nosotros lo que estamos diciendo es que se tiene que presentar en los presupuestos

del curso no en estos presupuestos ya se lo ha dicho también la señora lópez de ocariz tiene que ser en estos presupuestos y no aparecen no aparecen punto ahora los cien millónes los negoció usted con el gobierno no conmigo

pídaselos al gobierno nosotros estamos de acuerdo en que se pongan en que se pongan porque si aprobamos la ley la aprobamos toda incluida la disposición pero es que esos cien millónes una cosa es el dinero y otra cosa es la partida no confundamos yo no soy técnico en presupuestos

si uno hace una partida de subvenciones efectivamente tiene que aparecer una dotación de cien millónes

perdón si uno hace un instrumento que es un prestamo no tiene por qué aparecer

que el instituto vasco de finanzas y lo dijo la señora tapia que el instituto vasco de finanzas hará unos prestamos reintegrables y yo no sé lo que van a hacer porque en la ley de presupuestos no aparece

si técnicamente no tienen por qué aparecer cien millónes pues no me haga usted comulgar con ruedas de molino y no mezcle ni la ecología política

anteayer un compañero suyo el señor casanova dio certificados de buen ecologismo y a nuestro grupo no nos lo dio entonces

busquen a alguien que tenga el certificado de buen ecologismo que parece que solo lo tienen ustedes

qué vamos a hacer eskerrik asko becerra jauna

legebiltzarburu andrea labur labur creo que ya lo he explicado alguna vez en

dentro de veinte años vendrá algún miembro del grupo popular o lo que sea dentro de veinte años y dirá

hombre dónde va a pasar dónde va a parar perdón mire señor otero creo realmente

no me gusta tener que o hablar más de lo necesario soy una persona

hablando sobre un problema que realmente no existe

repite más de ocho veces nos dicen nos dicen nos dicen y dice cosas que nosotros ninguno de nosotros ni el señor azpiazu ni la señora tapia ni yo mismo les hemos dicho es decir usted crea el problema hace sus propias lecturas de cuál es el problema y viene aquí a plantearlo y nos acusa es decir bueno es que sí efectivamente respecto al plazo ustedes en su enmienda

lo que dice la ley en el ejercicio presupuestario inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la ley literal ah pero es que no ponen los cien millónes

y ahora es cuando yo bueno ahora procederemos votaremos y tal pero

puede sobre una ley es que es la ley la que tiene la prevalencia es que es la ley la que dice lo que dice y yo en la pnl digo cúmplase la ley

es decir es que no acabo de ver dónde está el problema de verdad se lo digo de verdad se lo digo lo que sí le digo es que gobernar no sé no sé si es eso que usted dice que dicen en esa serie de la que nos ha hecho

lo que sí sé es que es bastante más complicado que venir aquí a plantear que uno es el campeón mundial

sociales tecnológicos técnicos la señora tapia probablemente

dos decretos que son el desarrollo posterior de esta ley que le desarrollen al mismo tiempo la herramienta financiera

el día a día de la dirección de energía el día a día de la dirección de esto el día a día de la dirección de lo otro

hacer las cosas mucho más rápido en cualquier caso las hará dentro del plazo que establece la ley que es el ejercicio posterior

de la misma y en serio yo no sé si esto va de quién es más quién es menos

que para ustedes siempre seremos los menos los que menos hacemos y los que menos primeros no sé qué ahora si es verdad lo que dice esa serie

pues nosotros de vez en cuando nos la tomaremos ustedes está claro que no por eso

año tras año nos dan la espalda en el procedimiento presupuestario

y en otras pero en lugar de incidir en la vida del país en lugar de incidir en el futuro del país prefieren quedarse

los campeones pero en la irrelevancia pero bueno en fin eso ya es cosa suya

pero en cualquier caso sí que creo que no hace más por la transición energética por cualquier tema
el que más habla de transición energética o de cualquier tema sino el que más implica y el que más hace eskerrik asko eskerrik asko grajales jauna euskal talde popularra

pues muchas gracias por aclararnos que no son fiables muchas gracias por aclararnos que se comprometen a lo que no pueden ejecutar a lo que no pueden hacer muchas gracias usted mismo lo ha dicho y además han cogido cierto hábito no se ponen ni colorados mire

de finanzas tres partidas tres partidas participación en empresas finkatuz otra partida participaciones en empresas

ni un euro para financiar ayuntamientos ni un

euro para todo el dos mil veinte por lo tanto de qué están hablando es que es curioso

en la interpelación es que no sabemos cuándo van a necesitar los ayuntamientos claro porque el proyecto de ley que entra

no lo hicieron aquí te pillo aquí te mato metiendo enmiendas

el gobierno cuarenta enmiendas que ya le critique en su día la forma de tramitar esto un corta y pega para salvar el momento y cumplir con la directiva europea y por eso estamos como estamos y luego hablaba en la interpelación

qué legislatura llevamos de carga de acciones

pues no mientan tanto es que mienten y no se sonrojan tienen demasiado hábito como le decía nos ha dicho que no son fiables y yo coincido en esto con usted

a hermanas amigas primas vecinas hijas madres no están todas las que son ni son todas las que están aintzane

jenny rebollo mauren ada otuya deisy mendoza maget bobeau loredana andresku

egurrola andina reyes pereira alicia diecisiete meses

y otras muchas mujeres que han sido asesinadas en euskadi y algunas no están estamos

más igualitaria por construir y defender una convivencia incluyente basada en la defensa de los derechos humanos

alcanzados hasta la actualidad y afrontemos con nuevas medidas y políticas diversas las violencias machistas prevención atención protección reparación

integral en esta materia sin embargo creemos que desde el gobierno se ha puesto más énfasis en unas que en otras hasta el momento se ha dejado de alguna manera

y la reparación por eso hemos traído hoy esta iniciativa al parlamento y a todas las instituciones en las que tenemos representación en memoria de todas esas mujeres

y hoy nada desde las instituciones se están realizando algunas acciones en relación con la memoria pero todavía son puntuales dispersas y no están enmarcadas en una política pública de largo alcance

se puso el nombre de nagore laffage casasola a un parque de irún

una referencia clara de cómo a partir del dolor se puede hacer memoria y pedagogía decía en unas declaraciones aquí en irún

es un acto pequeño pero muy simbólico yo creo que para la sociedad es importante todo lo que no se ve se olvida a todo el mundo que pregunte ahora o dentro de unos años quién fue nagore se lo contarán

muy bien lo importante que es para un pueblo no olvidar visibilizar y llevar al espacio público y a la memoria colectiva a las víctimas y supervivientes de violencias

las violencias machistas son una vulneración de derechos humanos sistemática y estructural es decir es organizada y establecida dentro de la estructura social machista y por lo tanto aún protagonizada en numerosas ocasiones por personas concretas en lo que se llama relaciones privadas su explicación

con la sociedad y porque son una vulneración de derechos humanos es necesario hacer memoria histórica y colectiva reconocimiento y reparación para todas las víctimas

contra la convivencia y que tiene consecuencias muy graves para las mujeres para sus familias y para toda la sociedad

las cifras de la vergüenza esas que nos acercan a una realidad invisible

mujeres que fueron agredidas por su pareja o expareja

y trescientos ochenta y cinco mujeres más que sufrieron violencia sexual fuera del ámbito familiar

contra ellas en el periodo de un año doscientos veinticuatro mujeres más que en dos mil diecisiete y en el número de denuncias que sabemos que no están todas aumenta y este número denuncias aumenta porque las mujeres continúan conquistando derechos y libertades están estamos perdiendo el miedo a denunciar las violencias se organizan

autónomas o empleadas precarizadas pensionistas estudiantes etcétera se encuentran y tejen

voces y reivindicaciones las mujeres están dando saltos cualitativos y como digo avanzan y desbordan las formas tradicionales

la sociedad en su conjunto es cada vez más sensible y está más concienciada

son más las mujeres que deciden dar el paso para denunciar a pesar de que las instituciones todavía no están preparadas para darles una garantía de no revictimización

no reflejan repito no reflejan la totalidad de la realidad

cada día quince mujeres son agredidas en euskadi

agredidas en euskadi en definitiva se trata claramente de una constante y sistemática vulneración de los derechos humanos de la mitad de la población

investigadora de la universidad de valencia escribía sobre la necesidad de memoria sobre violencias machistas y decía generalmente

de memoria histórica se focalizan de nuevo en acontecimientos políticos que tuvieron una enorme repercusión social en su contexto y un carácter generalmente

las violencias derivadas de las opresiones de género son constantes y poco llamativas ya que no responden a un golpe de estado o a un suceso político concreto se necesita una memoria de las violencias sistemáticas y no solo de las violencias y opresiones sino más bien de las resistencias cotidianas individuales colectivas

la memoria es un instrumento para la transformación tiene el poder de contribuir al cambio del orden normativo porque posee la capacidad de

las identidades individuales y la acción colectiva así lo entendemos nosotras desde elkarrekin podemos y reconocemos que algún paso se ha dado en este sentido sin embargo no se ha conseguido hasta ahora situar a las víctimas en la memoria colectiva ni histórica

para transformar hay todavía un gran campo de trabajo por explorar y avanzar en políticas de memoria y reparación en este ámbito la reparación el reconocimiento y la memoria de las mujeres que han sufrido violencias machistas debe formar parte de la atención integral y son una herramienta fundamental para divulgar una cultura de derechos humanos y construir

acabamos de conmemorar el día internacional contra las violencias machistas

creemos que en estas fechas todos los partidos todas las representaciones políticas que estamos aquí debemos renovar nuestro compromiso firme con los derechos y libertades de todas las mujeres niñas adolescentes jóvenes y adultas y continuamos trabajando y continuaremos trabajando con propuestas e iniciativas concretas con acuerdos pequeños

a partir de esta iniciativa y del acuerdo que hemos alcanzado estamos dando creemos un gran paso adelante para comenzar

de memoria y reconocimiento imprescindible para avanzar hacia una sociedad libre de violencias machistas para avanzar hace hacia una euskadi libre de violencias machistas celebramos

y celebramos que este parlamento pasito a pasito demuestre su compromiso en la erradicación de las violencias machistas y la memoria de todas esas mujeres que hoy ya no están con nosotras

poco efectivamente conmemoramos el veinticinco de noviembre el día internacional

y creo que sí es un día obviamente para reafirmarnos en el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra esta lacra

no solo tiene que ser el compromiso que dure un día sino que obviamente se tiene que hacer extensible a todos los días del año y creo que también y es una afirmación que suelo hacer lo he hecho en esta tribuna y en numerosas declaraciones cuando hablo de esta cuestión

a toda la sociedad en su conjunto no solo a las mujeres sino

y desde luego que el éxito de que podamos ir combatiendo a esta lacra y dando pequeños pasos es un éxito y será un éxito colectivo de todos si logramos involucrar a toda la sociedad hace poco con ocasión

en un foro al que me invitaron de una asociación importante que trabaja en el ámbito nacional mujeres por la igualdad y la verdad es que fue una charla muy interesante porque estábamos personas

ámbitos y en esa mesa en ese foro se abordó el problema de la violencia de género desde distintas

sí que es cierto que hubo una coincidencia en aspectos fundamentales que debemos tener muy presentes cuando hablamos de la violencia

hablamos de visibilización hablamos del papel de la educación de educar en el respeto

y eso se hace desde luego con programas específicos desde el ámbito educativo

del problema y además en varias personas y teníamos además

del problema que está suponiendo también el uso no adecuado de las nuevas tecnologías

que obviamente como lo estamos también percibiendo además en alguna ponencia en este parlamento ese tipo de consumos sin duda también hace mella

comportamientos hablamos también de la importancia de la prevención hablamos también de la importancia de la protección y en este sentido

la ley veintisiete barra dos mil tres de treinta y uno de julio que reguló las órdenes de protección que configuró un estatuto de protección integral a las víctimas

competente las medidas cautelares precisas yo creo que esto sí supuso realmente un antes y un después también en la lucha contra la violencia de género otra cuestión importante también y otro hito importante es la ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género del dos mil cuatro pero sí que es cierto que pasados y transcurridos diez años el observatorio de violencia de género y el consejo general del poder judicial también bueno anunciaron la necesidad

poner en marcha y la necesidad de abordar esta cuestión con nuevas reformas legislativas así también tenemos que decir

que claramente con algunas de sus previsiones refuerza la protección a las víctimas

nuevo tipo de acoso hostigamiento y acecho castigar la divulgación no autorizada de imágenes cuando a alguien

situación consentida pero luego esa imagen se divulga y no solo a la persona que la divulga que ha participado en esa situación sino que luego cuando esa

en momentos posteriores esas imágenes el asunto de la prisión permanente revisable también en determinados supuestos que tienen que ver con la violencia

un asesinato también me parece importante señalar

porque fue de la mano del consenso y cuando han ido las cosas en consenso

han ido razonablemente bien y me parece importante el compromiso

en relación a la violencia de género cuando se ha suscrito este pacto

que reconoce y creo que también esta era una demanda reiterada

sobre todo por las personas expertas que trabajan en este tema a los menores como víctimas de violencia de género es que hasta ese momento

y eso llevaba simplemente a que los menores víctimas de una situación de violencia de género se quedarán por ejemplo sin ayudas creo que también eso

un paso bastante importante por lo tanto quiero concluir diciendo que si bien queda mucho por hacer yo creo que también es de justicia reconocer

los diversos partidos políticos hemos estado a la altura de las circunstancias arbitrando los mecanismos necesarios para combatir la violencia de genero

compartimos el fondo obviamente cómo no podemos compartir que se repare la situación de una víctima de violencia de género pero nos parecía más oportuno

iniciativa ir a la concreción y en ese sentido presentamos nuestra enmienda de totalidad por una parte pedimos al gobierno vasco que se remita

que modifica la ley para la igualdad todos sabemos que el compromiso de este gobierno era remitir un proyecto de ley específico para la erradicación de la violencia contra las mujeres

ha llegado a la conclusión de que es mejor modificar la ley de igualdad pero ese proyecto de ley que estaba comprometido para el segundo cuatrimestre de dos mil dieciocho todavía se ha aprobado en el consejo de gobierno y por lo tanto no ha sido remitido a esta cámara por lo tanto creemos que sobre todo teniendo en cuenta que la legislatura está

que el gobierno vasco aprobará ya este proyecto de ley de modificación de la ley de igualdad a la mayor brevedad posible

a la que hacía referencia yo creo que es importante reforzar todos los programas que tengan que ver con la prevención la sensibilización la atención y protección

también en el centro de las políticas contra la violencia de género a las políticas educativas desde el grupo popular también consideramos imprescindible reforzar todos los programas educativos y potenciar una educación en valores como el respeto la tolerancia solidaridad justicia e igualdad

de transacción porque obviamente nos sigue pareciendo un tanto genérica nos hubiera gustado que

recogido sea recogido la parte que hace una referencia al proyecto de ley de dos mil cinco de la remisión del citado proyecto de ley creo que es algo además que es lógico lo hemos también incorporado

debates sobre esta cuestión ya digo no vamos obviamente a votar en contra pero nos hubiera gustado también una mayor concreción en alguno de

artikulu bat idazten zuen gerra garaiko memoria historikoari buruz eta berak dio que una de las fórmulas para el recuerdo colectivo es la construcción de memoriales históricos grandes edificaciones o pequeñas placas conmemorativas

en un pasado pero qué entendemos por memoria histórica hasta dónde y a quién le vamos a ofrecer esta memoria son pocos

salvando alguna excepción están alejados del centro de las ciudades en ellos no se muestra la diversidad de la participación de las mujeres

arazoak suposatzen dituela pero en cambio sí que dice que es importante y tiene muy claro

a estas mujeres como víctimas también son muy importantes y que deben promoverse porque sirven como denuncia y reconocimiento del impacto diferencial de género que tienen

además de denunciar los horrores de la guerra la activista salvadoreña

actúan como espacios físicos de encuentro entre las víctimas que ayudan a reparar su dolor especialmente el de las familiares de desaparecidas y cumplen una función pedagógica para las generaciones futuras guzmán participó de lleno en la construcción del monumento

este fue liderado por mujeres víctimas por defensoras de derechos humanos y por activistas feministas ella dice nos organizamos después de que los firmantes de la paz desoyeran a las recomendaciones que hacía naciones unidas para construir el memorial quién estos procesos y eso es lo que traíamos en nuestros puntos cinco y seis uste dugu oso garrantzitsua dela herrietako mugimendu feministetan

para comentar pero julia monge recordaba que en dos mil dieciséis

se hizo una escultura que manejaba a las mujeres que resistieron a las ejecuciones extrajudiciales a los cortes de cabello

durante la guerra fue una iniciativa de la asociación de mujeres con memoria y su financiación fue autogestionada el memorial

amplias en las que guardan piedras piedras que llevan mensajes que previamente se han escrito por las vecinas o que han llegado de cualquier punto de euskal herria para monge es un memorial especial por lo participativo del proceso y porque permite reparar a las víctimas a la vez

en la transmisión en cambio como decía los procesos liderados por mujeres suelen encontrar trabas cuando hay que negociar con actores institucionales y políticos

del memorial a veces todas estas mujeres expertas que han trabajado estos procesos dicen que los lugares propuestos por las instituciones no coinciden con las denuncias o las demandas que hacen las mujeres

lugares céntricos y tranquilos como parques públicos

nos ofrecieron un cementerio para el monumento recuerda con enfado guzmán pero en la actualidad

en un lugar terapéutico al que acuden las víctimas pero en cambio cuando la construcción se hace desde arriba a abajo peligra la legitimidad del memorial es el caso del monumento a las mujeres de la memoria de chile avalado por el estado

pero que se encuentra prácticamente abandonado también es el caso del memorial a las víctimas de feminicidios en ciudad juárez se trata de un monumento que se enmarca dentro de la condena que la corte interamericana de derechos humanos impone al estado mexicano conforme a esta condena por un lado el estado debía indemnizar

y por otro realizar un acto público el dinero no se encuentra por ninguna parte y eso es lo que nosotras poníamos en nuestro segundo punto que la reparación sea económica para las personas que sobrevivieron y para los familiares

porque sin ningún tipo de ayuda económica sin ningún tipo de prestación para poder desarrollar esos proyectos de vida y poder desarrollar

que ellas mismas puedan participar en la elaboración de la necesidad de estos espacios porque sin ellas no es posible eta amaitzeko

gracias presidenta y buenos días otra vez a todos

a debate es verdad que normalmente estas iniciativas acaban con una votación en la que siempre sale un acuerdo unas veces con más que con más votos que otro y esta vez es verdad que nos gustaría que los votos a favor fueran más

y eh bildu en esta ocasión no está de acuerdo con lo que hemos pactado tres grupos parlamentarios tal y como comenzó su intervención el lehendakari respondiendo a la señora arana en una interpelación

en todas sus fases el gobierno vasco trabaja en todas aquellas áreas relacionadas con violencia machista es un tema transversal y son muchos los departamentos implicados

desde la prevención hasta acciones completas por lo tanto entendemos que el gobierno vasco y los partidos políticos aquí representados tenemos un compromiso que desde luego es innegable además esto se puede ampliar si miramos fuera de esta institución porque la sociedad vasca

con la reparación de todo lo que le sucede a las víctimas de violencia machista por supuesto todas las instituciones implicadas entendiendo a los ayuntamientos como uno de los gestores más importantes para ello y no hay más que hablar de lo que ha ocurrido esta semana con el tema de irún en el que desde luego la familia de nagore es la primera responsable de lo que ha sucedido

pero hay que reconocer que todos los partidos implicados en el ayuntamiento

esta iniciativa que ojalá fuera ampliada al resto de ayuntamientos vascos todas las actuaciones que hace la administración tienen algo que ver con esto

también hemos hablado y creo que nadie niega que efectivamente se están haciendo cosas todos buscamos impedir la revictimización

en cada una de las iniciativas que debatimos en esta cámara en euskadi se han hecho muchas cosas creo que es innegable pero cuando una y otra vez nos vemos obligadas a repetir estos debates efectivamente hay que reconocer que queda mucho por hacer tenemos pendiente la modificación de la ley de la que nos hablaba la señora garrido

al que nos remitía el lehendakari en aquel pleno y las medidas económicas que por supuesto

y comparto con la señora etxebarrieta que es muy complicado continuar o empezar tu proyecto de vida cuando has sido víctima

una vez más compartimos el fondo de la moción probablemente escuchando a quien propone la iniciativa casi las demás no debiéramos más que explicar el voto a favor o en contra porque aunque repetimos este tema siempre aparecen cosas nuevas siempre aparecen testimonios casi es no digo inventar pero es complicado preparar las iniciativas en lo que tiene que ver con violencias machistas la iniciativa de hoy tiene por objeto apuntalar las medidas

y también creo que en este marco está actuando el gobierno

escuchamos una y otra vez la necesidad de trabajar en el ámbito educativo

podemos trabajar en medidas económicas pero si no empezamos a trabajar en el ámbito educativo no terminaremos de acabar con eso en el segundo plan de coeducación para el sistema educativo vasco

ya se plantean objetivos estratégicos para la escuela del futuro después de la realización

la opinión del grupo socialista es que hay que seguir trabajando en todo pero debiéramos de focalizar los esfuerzos en el departamento de educación porque es ahí donde comienza el problema y es ahí donde

pero creo que eso está en el debe desde el grupo socialista apoyaremos el acuerdo alcanzado porque entendemos que este asunto

porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y a la vista está

y es nuestra responsabilidad trabajar en las políticas necesarias para erradicarlo porque dedicar esfuerzos a la memoria reconocimiento y reparación de violencia es un compromiso ético ya no solo político para mi grupo parlamentario por tanto esperar que algún día dejemos

debatir sobre este tema y esperar que en más de una ocasión porque no son muchas los acuerdos respecto a las iniciativas relativas a violencia machista acaben siendo

porque como decíamos hace unas semanas cuando participábamos cinco portavoces de esta cámara en un debate en torno a la política y las mujeres

porque este es un asunto de todos pero con el respeto de ellos

de entendernos nosotras porque estamos mucho más de acuerdo con todo aunque luego es difícil a la hora de redactar las enmiendas o redactar los acuerdos cuando debatimos y ponemos sobre la mesa lo que nos preocupa a todas nos preocupa lo mismo y aunque

en la víctima de este problema no hay más que ver los datos no hay más que ver las noticias y el porcentaje de mujeres desde luego es mucho más sangrante es un problema de todos pero nosotras es verdad que somos capaces a veces de humanizar la política y de llegar a acuerdos y ojalá en las próximas ocasiones la unanimidad sea el resultado de la votación

lo que debería ser común es decir el respeto hacia todas el reprobar todo tipo de violencia contra las mujeres por parte de toda la sociedad

es por ello que desde las instituciones también desde los distintos agentes asociaciones y en definitiva por parte de toda la sociedad debemos combatir este tipo de acciones de vulneración de derechos humanos que recaen sobre las mujeres solo por el mero hecho de serlo

sí gracias otra vez presidenta muy brevemente decía en mi primera intervención que empieza a ser un poco complicado preparar las intervenciones para hablar de todo lo que tiene que ver

creo que como decía es más lo que nos une que lo que nos separa y siempre acabamos demandando que esto tiene que estar unido a financiación económica porque luego muchas de las políticas quedan en las tribunas quedan en los programas electorales y acaba siendo muy complicado llevarlas a cabo creo que igual me excedo haciendo no sé casi ni si viene mucho a cuento decirlo pero creo que visto que en todos los plenos ordinarios hablamos de esto y siempre suelen ser por iniciativa

podría ser el momento de que este parlamento aprobara un pacto de país contra la violencia machista siempre hemos hablado todos los partidos políticos bien de lo que se hizo en el congreso de los diputados

todos los departamentos cada uno en lo que le compete acaba haciendo cosas en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y quizás sería el momento de emplazar al lehendakari a que liderara este pacto de país contra la violencia machista porque creo que cuando acabamos desgranando tanto un tema

que muchas veces son los medios de comunicación por supuesto en ese pacto de país tendría protagonismo

el gobierno en la responsabilidad que le corresponde pero quizás sería el momento de empezar a dar un paso más allá de seguir debatiendo y debatiendo iniciativas que no es que para mi partido no tengan

pues a ver si somos capaces de unirnos en esto que parece que nos preocupa a todos eskerrik asko rojo andrea eztabaida amaituta

hoy traemos a esta cámara la noticia seguramente más importante de cara al futuro

el consejo regulador y no solamente traemos el registro sino la actitud no solo ante las bodegas alavesas del propio consejo regulador sino también ante las instituciones vascas

y con graves consecuencias también de cara al futuro una usurpación sino un robo de algo más que una marca comercial una usurpación de un territorio

porque aquí no se trata de la gestión de una marca comercial de una marca más aquí se ponen en cuestión estos cinco siglos de historia

se pone en cuestión el nombre de la comarca y de quienes viven y trabajan allá

es una comarca histórica que supone el diez por ciento de álava comarca vasca que no se nos olvide y hoy traemos esta moción a aquí porque creemos que es una noticia muy importante si no la más si no la más y vamos a denunciar la actitud inadmisible el consejo regulador

y lo decía en euskera y costaba entenderlo pero lo digo en castellano para que no se me quede con la sensación de no haberlo dicho el consejo regulador ataca

pero no por intereses personales no no no son intereses empresariales y efectivamente económicos veinte años que esta marca ya estaba registra por el consejo regulador y que ahora

todo ha estado tranquilo pero han pasado veinte años en los que la situación de rioja alavesa

empeorando poco a poco y yo diría que estamos en una situación ya bastante desesperada en el año mil novecientos noventa y seis había setecientos veinte bodegas más o menos

hay la mitad en el dos mil diecinueve en este mismo año en el que estamos en el que ya quedan pocas han desaparecido ya veinte bodegas familiares

nadie se ha preocupado de esta marca rioja alavesa pero qué pasa que la situación se complica y hay un grupo de bodegas familiares

que decide que esto ya no puede ser que sus intereses en el consejo regulador no están representados como deberían y que van a dar un paso ante la desesperación ante la incertidumbre ante la debilidad de estos grandes grupos y de este grupo rioja

hace dos años este movimiento se va al consejo regulador también con el aval del gobierno vasco y plantean una diferenciación clara una diferenciación

y no tanto en la cantidad esto pasa en agosto del dos mil diecisiete y el consejo regulador ante la solicitud de una nueva denominación de origen que sería viñedos de álava bueno pues en primer momento dice que sí

hace un gesto de buena voluntad y aprueba ese mismo día la posibilidad de que bueno que se diferencien

bien que se diferencien todo parecía ir bien nadie se movía hasta que al día siguiente efectivamente alguien se mueve y el consejo regulador no

porque piensa que vienen curvas y efectivamente vienen curvas la actitud del consejo regulador para nada es de buena voluntad

y ese registro en europa no solamente dice que no es de buena voluntad sino que es muy mala y que no hace las cosas de frente y que también tiene miedo

este modelo económico y empresarial legítimo absolutamente sí pero no familiar ni no apostando por la calidad alavesa en este caso diferenciado

la cuadrilla rioja alavesa un organismo sin recursos técnicos sin recursos políticos pero sin recursos económicos tampoco recurre recurre

de abogados y en agosto definitivamente se rechazan todos sus recursos

el consejo regulador es dueño y señor hoy en día de la marca rioja alavesa decía antes que han ninguneado a las instituciones y además es que hasta hace poco se hablaba de bueno pues hasta ahora se oía al diputado general y también aquí al gobierno vasco no podemos perder nuestro nombre rioja alavesa bueno tenemos

si hay que recuperarlo es porque efectivamente ya está perdido llevaba veinte años pero ahora ya

tengo aquí apuntado hablar del consejo regulador rioja y su actitud

la extralimitación que está planteando la actitud prepotente yo diría que chulesca incluso y provocadora provocadora poniendo en un brete no solamente al gobierno vasco también a la diputación pero cómo no a esas bodegas que pelean todos los días

por seguir sobreviviendo pelean por seguir sobreviviendo

extralimitando pero es que no es nada nuevo no es nada nuevo lo sufren las bodegas lo sufren quienes viven y trabajan en rioja alavesa y ahora ya también el gobierno vasco domina el consejo regulador es sencillo los grandes iba a decir los grandes empresarios pero no me estaría equivocando las grandes empresas

y desde luego no permite ningún movimiento por muy pequeño que sea porque sean pocas bodegas que sean alaveses que sean pequeñitos qué

pues se ve perfectamente que los pasos del consejo regulador siempre siempre tienen una segunda parte desde luego lo decía hace un momento el consejo regulador tiene una estrategia legítima yo eso no lo puedo negar eso es así pero es antagónica con el modelo familiar con el modelo

bueno pues el modelo que el consejo regulador plantea hoy es anti insostenible no sé si está ni siquiera bien dicho las bodegas familiares de rioja alavesa plantean diferenciarse plantean calidad

ya no sirve por eso la interpelación mía de hace quince días exactos o tres semanas por ahí

para recuperar esa marca era muy sencillo además yo creo que en una línea lo decía todo pedíamos medios técnicos jurídicos

por cierto espero que no sea tarde que cuando vayamos a recuperar la marca rioja alavesa

estar unidos a rioja espero que no sea tarde pero la actitud como poco me pareció preocupante y la interpelación que traemos hoy aquí es pues porque la reacción de la consejera tapia

no la tenemos en nuestras manos la tiene una empresa privada bueno hasta ese punto me alegré también la noté un poco incómoda porque es verdad que

efectivamente es una situación un poco incómoda porque no es fácil para el gobierno

es dueño y señor no solamente de la marca sino de tantas otras cosas también vi una actitud un punto sumisa diría yo un punto sumisa un poco ingenua porque hablaba de buena fe no

una sensación de bueno no les vamos a molestar mucho venga vamos a pedirles que nos devuelvan la marca con buena fe y vamos a ser buenistas

así que usted apelaba señora tapia a la buena fe del consejo regulador a mí me suena un poco a broma porque

porque falta pedirles permiso y ahora me recuerdo a las camisetas estas del alavés o me recuerdo también en los partidos del baskonia cómo hay grandes carteles que pone rioja alavesa o los

es porque el consejo regulador nos dejó poner rioja alavesa en esas camisetas

nadie se pone esas camisetas entonces vayamos un poco más allá

hace falta pedirles buena fe ya solo nos falta pedirles perdón es que es lo único que nos falta entonces por eso la moción de hoy porque a las grandes empresas a los grandes marqueses a los condes a los reyes

entonces la cosa se complica y no sé por qué no tomamos las decisiones y no apostamos porque igual otro modelo también es posible que no digo que sea el único no seguramente serán compatibles pero defendamos que los pueblos de rioja alavesa sigan vivos ayer por la tarde yo estuve en rioja alavesa

las cosas están muy complicadas y las partes políticas no las estáis viendo

dinero encima de la mesa no os estáis jugando las habichuelas ahí nosotros sí y no sabemos cuánto va a durar esto

muchísimo nos dijeron la comarca se está liquidando y dije pero qué me estáis contando

si es nuestro nuestra bueno voy a decir una barbaridad es nuestra excelencia es que es nuestra excelencia

o sea hoy aquí no solamente recuperar la marca sino que pongamos a rioja alavesa en el punto que se merece así que yo voy a ir acabando porque

el gobierno vasco tiene que poner medidas jurídicas efectivamente para recuperar esa marca tiene que poner la parte técnica porque le corresponde pero yo también le pediría que ponga medios políticos no solo con la marca que eso es algo urgente porque la cuadrilla de rioja alavesa no puede actuar en algo que no es ni siquiera de su competencia pero que no tiene capacidad yo le pediría que defienda a ultranza los intereses de los y las riojanoalaveses riojanoalavesas porque son vascos son vascas tan sencillo como eso

están hay olvidados no no son parte nuestra y además

lo máximo que podamos las decisiones que se tomen en aquella comarca primero porque no son decisiones personales son decisiones empresariales y como tales yo creo que al gobierno le corresponde proteger

porque el futuro de rioja alavesa yo creo que está lejos del futuro de la rioja y voy a acabar con una cosa que tengo aquí que me lo he encontrado cuando he llegado a la mañana

y es un pasquín lleno de botellas de lo maravilloso que es rioja alavesa

vinos de rioja memorable cosecha fijo el consejo regulador prevé que la cosecha de dos mil diecinueve será recordada en la historia yo espero que sea recordada en la historia no solamente porque la cosecha va a ser excelente que de eso no tengo ninguna duda

compartimos la preocupación de la iniciativa compartimos la preocupación por la cual

alavesa que nació como marca para proteger los vinos de rioja alavesa para promocionarlos para extender su comercio por el mundo en estos momentos está en una posición de incertidumbre porque

intención un interés por excederse en lo que significa esta protección que en su día se le daba a esta marca como digo referenciada exclusivamente a la promoción del vino empiezan a aparecer intereses comerciales diferentes que van más allá que invaden otros sectores de la actividad económica de la actividad productiva y obviamente esto es una preocupación para las instituciones y por eso compartimos

esta preocupación del paso cualitativo que ha dado el consejo regulador de rioja y compartimos también

foral de álava de la cuadrilla de rioja alavesa del conjunto de instituciones que están tratando de encontrar una solución

problema ciertamente desde hace unos cuantos años los desencuentros con el consejo regulador son importantes tenemos muchos problemas y muchos frentes abiertos lo tenemos en relación a cómo se evalúa la calidad de los vinos de toda la denominación lo tenemos en relación a qué es más importante si una política de calidad

o cómo se combinan ambas cosas donde hay producción puede haber precio pero donde hay calidad tiene que haber también precio otro tipo de precio y otro tipo de valor por precisamente esa calidad

ha habido muchas iniciativas que han generado confusión e incertidumbre en el sector recordaré que hemos hablado de viñedos de álava de bodegas de euskadi

y por lo tanto creo que estamos ante una época bastante decadente que convendría reconducirla en su conjunto

es más importante la política que la judicialización del problema en esa tesis está el gobierno vasco una tesis que nosotros obviamente apoyamos creemos que los problemas con el consejo

hay que tratarlos por la vía de la política por la vía del diálogo de buscar entendimientos entre otras cosas porque por lo menos los socialistas no cuestionamos para nada la pertenencia al consejo regulador nos parece que es imprescindible que es fundamental para la promoción económica de este sector y de toda la comarca y también

fundamental en el empleo y en la economía de álava y del país vasco

esa pertenencia pero sí creemos que hay factores internos de relaciones internas y además factores externos

económica y productiva de este sector estamos en un periodo en el que a todas las tensiones internas acumula el brexit se acumulan los aranceles se acumulan elementos que ya no están muy en nuestra mano para poder enfrentarnos a ellos aunque lo hacemos y aunque debemos de poner todas las herramientas en esa disposición pero sabemos que son problemas y circunstancias que nos sobrepasan bastante

una capacidad de actuación en ámbitos que son superiores al de este parlamento vasco pero lo quiero señalar porque efectivamente generan también un problema de tensión sobre el sector hay que decir también que rioja alavesa

vinícola de rioja alavesa no es un sector homogéneo no todo el mundo piensa igual no todas las bodegas piensan igual basta con decir que hay varias asociaciones

aspecto de la promoción del vino también que han confrontado formas de ver y de enfocar a este sector

también dentro de rioja alavesa la producción varía en su cantidad y en su calidad dependiendo de las zonas es decir que no estamos ante un sector que sea

que tengan los mismos intereses no son lo mismo las pequeñas bodegas que las grandes bodegas no son lo mismo las bodegas con una determinada calidad y una determinada proyección en lo que es su capacidad de penetrar en el mercado

y que provienen del interior o que provienen también de otras alianzas comerciales

tenemos un sin fin de frentes abiertos y además tenemos como estamos tratando un sector que es pujante que es importante que genera

y mucha atención social a esa comarca y que lo aporta hacia álava y hacia y por eso tratar este asunto tiene una importancia grande y es muy razonable que se haya traído a este parlamento yo creo que lo más importante de este debate es que estamos

tanto el grupo que ha presentado la iniciativa como los que hemos presentado enmienda estamos de acuerdo en una enmienda transaccional que espero sea apoyada por los grupos no enmendantes creo que aquí hay una unidad de criterio y una unidad de acción para que

más en concreto siga trabajando como lo viene haciendo en defensa de esta marca que como su mismo nombre indica

su uso su utilización el valor añadido que pueda tener le corresponde al conjunto

al territorio pero también al país y bueno yo creo que este espaldarazo que vamos a dar a esta iniciativa y a esta enmienda transaccional podemos decir que este parlamento tiene una unidad de acción para tratar de defender la recuperación de esa marca

más allá de las cosas que esté haciendo el consejo regulador es apelar al diálogo

espero que ese diálogo y ese entendimiento dé alguna satisfacción y no sea necesario ir

judicial pero bueno en cualquier caso en este momento eso obviamente también está abierto y por eso también este parlamento se ha definido al respecto y se ha posicionado

socialista y me gustaría que empezáramos a rebajar un poco el tono en relación a las confrontaciones y enfrentamientos entre

y rioja como denominación me gustaría que entráramos en un campo más

más razonable de más entendimiento yo apuesto por eso creo que el consejo regulador sigue siendo fundamental y decisivo para la promoción de nuestros vinos y que quizás hay que bajarle tensión política hay que bajar tensión ideológica hay que

con una sola voz ni de una forma homogénea porque los intereses y las diferenciaciones entre nosotros y de nosotros con el consejo y por eso no veo más solución para abordar todos estos frentes internos y externos que el diálogo la colaboración la cooperación la armonía

diplomática que a su vez tiene una base muy importante y es la propia existencia del vino todos sabemos que en torno al vino se han generado históricamente grandes

es un gran embajador de las relaciones personales y de las relaciones sociales y bueno a ver si

y rioja alavesa somos capaces de arreglar este problema muchas gracias eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak molina andrea zurea da hitza

las últimas semanas así que supongo que tampoco vamos a oír nada nuevo desde luego ya les advierto que yo tampoco voy a contar nada revelador porque ya conocen nuestra posición hace poco escuchábamos en la interpelación que la señora lópez de arroyabe

que esta le daba que por cierto era bastante clarificadora ya que apuntaba el trabajo que habían realizado las instituciones para frenar la apropiación que el consejo regulador de origen rioja ha hecho de la marca rioja alavesa en europa también hemos podido escuchar en las juntas generales de álava las explicaciones dadas por el diputado general sobre este asunto

en esa cámara por lo tanto conocemos perfectamente la situación y la postura

ahora bien conviene recordar cuál ha sido el periplo de la marca durante estos años el consejo regulador

inscribió hace veinte años el nombre de rioja alavesa para uso alimentario y vinos en el estado es decir en la categoría treinta y tres y es verdad que desde entonces nadie ha hecho nada

ni siquiera el grupo proponente pero hace poco el consejo iba más allá y trató de registrar la marca para otros usos que nada tienen que ver con el vino como la ropa

que se aleja del objetivo que tiene el consejo regulador de proteger promover y comercializar el vino de rioja alavesa y controlar su productividad y calidad

la diputación foral de álava ganó dos recursos al consejo regulador en el estado donde pretendía registrar la marca para productos de ropa y calzado y de servicios de entretenimiento es decir la clase veinticinco y cuarenta y uno y gracias a la labor de diputación el registro de marcas denegó esa inscripción y a día de hoy su uso no pertenece

en su cerrazón el consejo decidió solicitar también a la oficina de propiedad intelectual de la unión europea la inscripción del nombre y la marca de rioja alavesa para lo mismo es decir

y ante semejante despropósito las instituciones vascas de nuevo desde el primer momento y de forma coordinada

así se decidió entre todas las instituciones presentó una solicitud de oposición al registro europeo de la marca lamentablemente no siempre se gana como en la vida y la oficina falló en contra de las alegaciones presentadas y dejando del consejo el uso exclusivo de la marca rioja alavesa en europa para nuestro grupo es incomprensible consideramos que no tiene sentido ampliar ese registro de marca

para productos de merchandising café té etcétera que nada tienen que ver con el vino

y venta de vino en el consejo y una mercantilización de una marca que identifica a una comarca administrativa del territorio alavés

regulador que además de exigir que se ceda el registro de buena fe como indicó como se debe iniciar toda negociación nada que ver con la sumisión señora lópez de arroyabe

que sean necesarias habrá que realizar un estudio desde la perspectiva jurídica histórica administrativa

de que seguirán trabajando para recuperar la marca para que sea utilizada bajo la tutela de las instituciones y empresas vascas y lo harán como hasta ahora con discreción alejados de los titulares en coordinación y utilizando el asesoramiento legal y jurídico

y de todo esto trataba la enmienda que presentamos junto a los socialistas vascos que se parecía a la moción presentada por eh bildu y digo que se parecía porque instábamos a lo mismo pero con matices matices que hay que resaltar porque son los que

era importante recalcar que el gobierno vasco continua trabajando porque lo está haciendo desde el minuto uno

y se sigue haciendo de hecho gracias a aquel movimiento el consejo regulador no tiene ahora mismo la marca registrada dentro del estado aunque desgraciadamente todavía la mantiene en europa eta gure

gracias señora presidenta consejera consejeros señorías repasada la interpelación que hizo la señora lopez de arroyabe me sorprendió

decir que podemos hablar de rioja alavesa como una de las tres zonas de la denominación de origen calificada rioja

oriental algo por ejemplo que no podemos hacer de la denominación de origen idiazabal verdad que también afecta a varias comunidades autónomas y a los tres territorios del país vasco no podemos hablar de idiazabal de álava ni de idiazabal de bizkaia ni idiazabal de gipuzkoa

alavesa sí que me gustaría tener más visible el nombre de

sí que me gustaría tenerlo eso que este usted llama tabú

está en una zona extendida en poco más de trescientos kilómetros cuadrados del sur de álava con unas características especiales de subsuelos no que son pues el arcillo calcáreos que le dan una calidad diferenciada a sus vinos

un valor económico complementario a la propia actividad vitivinícola además de valores naturales culturales históricos en rioja

de viñedos de uva tinta y blanca con un rendimiento de siete mil ciento noventa y seis kilos por hectárea me refiero reflejado esto en el anuario

el número total de bodegas inscritas en la dominación de origen rioja en dos mil dieciocho era trescientos cuarenta que representan casi la mitad de las bodegas totales de esta denominación que son setecientos ochenta y uno

empleos directos e indirectos dependiendo de las épocas pero bueno una media de

esto es la marca rioja alavesa además de todos sus productores y todo el entorno

ustedes mismos la rioja alavesa es presente es futuro única actividad agraria donde existe relevo generacional una comarca ágil activa con las dificultades propias de cualquier actividad incluidas las climáticas

diversas circunstancias que rodean a una actividad económica como en esta pues como el otro día hablábamos del brexit y otras

expectantes ante lo que pueda ser de muy buena en calidad esto daría un empuje importante a sus ventas

los vinos de denominación de origen rioja están presentes en ciento treinta países pero en dos mil dieciocho sus ventas han bajado un siete coma tres por ciento y esto sí que es un problema problema gordo un problema importante

consumo del vino de rioja alavesa en bizkaia y en gipuzkoa en sus capitales en bilbao y san sebastián y esto

que mira para otro lado que le hemos insistido en esta cámara multitud de veces para que haga una promoción del entorno de los vinos de rioja alavesa y no lo hace no lo hace

vino de rioja alavesa tabú solo un doce por ciento del vino que se consume en bizkaia y en gipuzkoa es de rioja alavesa

ni a la señora tapia ni a los grupos que apoyan al gobierno los problemas que están pasando los trabajadores del sector vitivinícola en la negociación del convenio colectivo

multitud de empresas de convenios de negociaciones de convenios sectoriales

el anterior convenio finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho en estos momentos siguen bloqueadas las negociaciones para el próximo convenio

ninguna iniciativa me da la impresión de que bildu con esta iniciativa viene a competir con el pnv en el lodazal viejo y casposo de a la gresca con el consejo regulador de la denominación de origen rioja un pnv podemizado que le importa el titular de mañana nada más no le importa más allá consejo en el que están representados el sector vitivinícola alavés abra asociación de pequeñas bodegas uaga productores araes agrupación de bodegas portadoras

el propio gobierno vasco el ministerio de agricultura las comunidades de rioja y de navarra y ningún representante se ha opuesto

la marca rioja alavesa para poder comercializar el producto

saben algo más que todos nosotros que hablamos bastante de oídas saben los productores presentes en el consejo regulador que tienen

calificada rioja en los mercados la realización de acciones de difusión

y el registro de las marcas signos distintivos nombres de

prevista en la materia el consejo regulador ha registrado la marca rioja y la de las subzonas rioja alavesa rioja oriental y rioja alta en más de cuarenta países

lo sabe el grupo socialista igual que lo exige a esta denominación se lo exige a otras denominaciones hacía la referencia de la denominación de origen idiazabal

de nada pero sí llevan txapela sí sí son de los de casa vale

saben perfectamente que el consejo regulador hace su trabajo amparado por la ley y eso ya le han dicho los tribunales por lo tanto por qué siguen enredando si hay alguna diferencia de incumplimiento pues están tribunales se ha dirimido cuando

es así es que hay un interés en ultrajar la marca rioja alavesa y maltratar sus vinos porque les molesta yo creo

qué pasó se hizo algo cuando nombraron capital del vino a bilbao no todos callados era bilbao

tiene méritos que beben vino de rioja de rioja rioja ese es el mérito ah no sabía

acude a los plenos del consejo regulador y no han puesto ninguna objeción ninguna objeción

socialistas tampoco tienen o no han manifestado objeción alguna el representante del gobierno vasco

por qué será hace dos años que se registraron estas marcas

supuesto problema nadie ha dicho nada en estos dos años y como les decía

la ley o parece que se está cumpliendo la ley y como les decía en aquello que no se cumpla se va a los tribunales es el camino

una exhaustiva protección del nombre amparado por la denominación de origen registrando a tal fin las correspondientes marcas nombres de dominios de internet y otros derechos de propiedad industrial que puedan complementar la protección prevista para la legislación en esta materia

a su alcance para defender el nombre protegido por la denominación de origen frente a su utilización

actos de competencia desleal u otros usos indebidos ese es la ley y como le digo yo si además de registrar la marca del vino pues ustedes dicen que hay otros parámetros pues está la justicia desde luego nosotros nos vamos a abstener ante la enmienda de transacción porque creemos

y yo le recalcaría por favor vamos a poner en valor lo que tenemos que tenemos mucho entorno muy próximo que dice que nos quiere mucho
pero nos arrebata todo lo que puede eskerrik asko lópez ocariz andrea

horretarako bada benetan ez du merezi la cuestión el debate real que deberíamos afrontar hoy y que bueno pues por lo que yo he visto hasta ahora en las intervenciones no se ha afrontado es para qué queremos una marca diferenciada

también tengo que decir que nos gustaba más la original de eh bildu pero si nos quedamos en el debate superficial pues seguramente no estaremos avanzando hacia el debate real evidentemente a nuestro grupo nos gustaría que la misma unanimidad tenemos en la necesidad de que la cuadrilla de laguardia y rioja alavesa recupere una marca que nunca debería haber perdido y que cuente para ello con la colaboración de las instituciones vascas

se produjera también para definir para qué queremos esta marca

si lo que buscamos es competir con una nueva marca con la marca rioja alavesa que es conocida en el mundo entero o en casi todo el mundo excepto en bilbao

entonces esta iniciativa está condenada al fracaso ahora bien si buscamos una marca nueva si buscamos recuperar la marca rioja alavesa para tener una marca que subraye

la sostenibilidad de una viticultura a ser posible ecológica el defender unas bodegas pequeñas y arraigadas en la comarca

y comercializar aquí en circuitos cortos incluso hasta bilbao entonces nuestro grupo apoyará esa propuesta de lo contrario estamos

de alguna manera romper el debate pero sí dejar constancia de que el debate exclusivamente sobre la propiedad de la marca se queda corto lo que tenemos que saber es para qué queremos esa marca y ese es el debate que nos gustaría que se produjera más tarde o más temprano tanto en este parlamento como en las juntas generales como en todo el territorio de rioja alavesa eskerrik asko

tengo que decir que me alegra por un lado compartir la preocupación porque de hecho esa es parte de la solución y como políticos y políticas lo que nos corresponde en todo caso es buscar soluciones

no nos corresponde juzgar qué quieren hacer empresarialmente nos corresponde facilitar y yo creo que en eso estamos todos y todas de acuerdo en esta cámara no por eso la iniciativa de hoy

pero porque tiene doble fondo podríamos decir no

y la marca rioja alavesa tiene que ser nuestra porque podremos facilitar elegir el tipo de modelo hay dos modelos absolutamente diferenciados pero todo lo dirige el consejo regulador así que difícilmente podremos diferenciarnos

que busca beneficios que busca cantidad y que la calidad pues bueno la podemos negociar hay otro que es de pequeñas bodegas ancladas en el territorio que de momento pueblan

las más infravaloradas y las que más difícil lo tienen para competir en ese

que lo que hoy veníamos a pedir al gobierno es por un lado recuperar el nombre porque es que así debe ser porque no puede ser otra manera y porque se lo debemos a la comarca y a las gentes que viven allá

ese otro modelo bueno basado en la calidad no que ahora ya sí se está poniendo en cuestión

es imposible buscar un relevo generacional porque es imposible acceder a la tierra porque es carísimo entrar en ese mercado y porque ya ponerte a elaborar y competir con esas grandes empresas es casi imposible

y la diputación foral de álava que en eso sí tiene competencias lo sabe de primera mano desde luego que el gobierno vasco hasta ahora bueno los dos últimos años ha estado ausente eso yo creo que nadie lo ha podido decir porque yo lo he oído hoy otra vez en este atril también lo escuché el día de la interpelación para el vino

el gobierno vasco sabe de esa inferioridad de fuerzas en el consejo regulador porque la inferioridad de fuerzas se mide en número de votos

diecisiete sabemos de la inferioridad de fuerzas david contra goliat ahí no se puede hacer y es más la inscripción de la marca rioja alavesa ni siquiera se llevó a pleno ni siquiera se votó

diecisiete votos frente a doscientos poco había que hacer pero es que ni siquiera se llevó entonces bueno

la actitud del consejo regulador está clara y yo creo que la actitud proactiva en defensa de rioja alavesa del gobierno yo ya la estoy dando por hecha porque de hecho la moción que vamos a presentar hoy y que se aprueba hoy

ser más ambiciosa y pero entendía que pasaba por encima del partidismo y que hoy sí que necesitamos un acuerdo en general para sacar adelante y para defender una comarca vasca rioja alavesa por encima de cualquier otro interés partidista así que voy acabando

el vino nos une nos guste o no el vino nos une aunque el partido popular hoy se abstenga

eskerrik asko lópez de arroyabe andrea prieto jauna bertatik presidenta desde el escaño porque es simplemente

la marca rioja alavesa existe y existe desde hace muchos años y funciona dentro del consejo regulador y hasta ahora ha estado protegida como marca en relación a la promoción del vino y además cuando se ha intentado que esa promoción fuese a otros sectores o a otras actividades de la economía

recuperar el paso adelante que ha dado el consejo regulador en relación a la marca rioja alavesa que la ha querido registrar para poder colocarla ante otro tipo de actividades que ya no están relacionadas con el vino sino que están relacionadas con

la actividad económica que quisieran sabiendo que esta es una marca que representa también a una comarca y que forma parte de un país y que por lo tanto tiene una identidad superior a la que se refiere a la promoción del vino este es el conflicto en el que estamos no se trata de inventar una nueva marca ya existe

de rioja alavesa dentro de la denominación de origen rioja y queremos que siga siendo así pero no queremos que esto pase a un escenario

comercial y económica por parte del consejo regulador que no es acorde a ninguno de los fines ni por los que existe el sector

señora lópez de ocariz si estamos de acuerdo perdón lópez de arroyabe

sobre este tema pero no me niegue los pasos que ha dado el gobierno vasco para frenar esta situación y encima es que le insisto que los sigue dando no porque encima todavía hay plazo recurrir ese recurso valga la redundancia y a mí sí que me gustaría apartar del debate las cuestiones aquí sobre las ventas sobre la denominación sobre la situación de las bodegas que está claro que hay que abordar e incluso sería interesante como decía el señor becerra hacer una reflexión no pero el debate de hoy

a desviar no la señora lópez de ocariz ahora sí ustedes pusieron el grito en el cielo cuando

de su asociación por qué no lo ponen cuando el consejo se adueña del nombre de

con el vino también bueno habla de que acude el representante o deja de acudir bueno eso también ya lo

pero es que además da igual es que no tiene voto el representante por lo tanto pueden decir lo que quieran porque no puede votar también ha dicho que el objetivo del consejo regulador es la defensa del producto protegido totalmente de acuerdo pero es su tarea acaso proteger una donde ponga rioja alavesa o un fular estampado con rioja alavesa no verdad pues entonces

el vino totalmente de acuerdo pero sin dejarnos pisar eskerrik asko eskerrik asko molina andrea lopez de ocariz andrea zurea da hitza

creemos desde el grupo popular que la marca rioja y la marca rioja alavesa pertenece a los viticultores de bodegas de rioja alavesa no desde el grupo popular creemos firmemente que juntos somos más que la marca nos identifica en el mundo

supondría la salida de nuestras bodegas de la denominación de origen rioja que es lo que quieren ustedes que lo han dicho muchas veces por activa y por pasiva y enredan y enredan

también exigimos al consejo regulador y al gobierno vasco una mayor promoción claro que sí está entre sus funciones y lo vamos a exigir de los vinos de rioja alavesa tanto a nivel internacional y local no puede ser que en bilbao y san sebastián el consumo de rioja alavesa solo sea de un doce por ciento desde el partido popular siempre hemos apostado por rioja alavesa hace veinte años apostamos por el regadío ahí está después apostamos y mejoramos y arreglamos la chapuza de regadío que dejaron en lanciego ahí está el éxito

rabanera hoy en día es el mayor destino turístico de álava

porque es un gran tesoro y para ello ponemos en marcha ideas

ustedes además de enredar están dispuestos a reforzar la denominación de origen rioja y rioja alavesa están dispuestos

una una me puede decir el gobierno vasco por qué lleva desde el año dos mil catorce sin aparecer la aportación que tiene que hacer en el presupuesto al consejo regulador puede decir puede explicar

ni tiene la comunidad de la rioja pero saben negociar saben estar saben hablar saben dialogar

esa es la cuestión además de llamar la atención de ejercer de díscolo de no aparecer en los plenos qué aportan ustedes en el consejo regulador qué aportan y les propongo un reto mire

al final finalmente vamos a votar favorablemente a la iniciativa

podemos vemos oportuno tener un mapa

un mapa sobre la diversidad lingüística en la comunidad autónoma del país vasco que sería diferente de un mapa sociolingüístico que más bien va encaminada a saber la situación de las dos lenguas oficiales efectivamente también creemos que la situación del país vasco es muy cambiante y no tiene nada que ver con la situación de hace unos años se hablan muchísimos idiomas aparte también de los idiomas

tener una radiografía de esa situación y por lo tanto votaremos a favor creemos que también además como se ha dicho aquí por parte de la proponente tenemos ya también una experiencia que se está haciendo en la diputación de gipuzkoa impulsada

positivo tener esa radiografía lingüística del conjunto de las lenguas

hori lortzeko por tanto a la vista de que en euskadi

diversa gente que ha nacido aquí pero que también

orígenes diversos pues es importante que intentemos hacer de euskadi un lugar como decía

convivir de manera plural de manera diversa respetando la cultura respetando las lenguas incluso haciendo ver que en euskadi también tenemos una lengua y que pueden convivir esas lenguas esas culturas tranquilamente se trata de enriquecernos mutuamente

y de alguna manera de aprender también de las circunstancias y de todo lo que nos rodea en nuestro día a día por tanto dentro de esa convivencia

entendemos que es muy positivo que se hagan estudios de este tipo y el modelo del estudio que se ha hecho en gipuzkoa creo que sirve de mucho sirve para saber cuál es la situación

para reorientar nuestras políticas para hacer un análisis de la situación actual de esas políticas y tener la posibilidad de ver con perspectiva de futuro qué modificaciones qué cambios qué adaptaciones debemos de hacer para que euskadi no pierda ese calificativo

de lugar donde se convive en todos los aspectos un lugar como decía que recibe

con los brazos abiertos y que es capaz incluso de mostrar la cultura que tenemos la lengua la identidad que tenemos de acogerles y de hacer suya también

que ellos hagan suya nuestra cultura por tanto en esta cuestión tenemos una buena oportunidad una puerta que se abre a buscar más riqueza

competitivos a conocer otros mundos otras culturas y también otras realidades económicas en las que buscar nichos de mercado educativa porque también a través de este estudio podremos mejorar nuestro sistema educativo mejorarlo como decía generar sinergias que generen una riqueza y que nos permitan enriquecernos cultural educativamente a toda la sociedad en definitiva pues también conseguir mejorar nuestros valores y mejorar nuestra convivencia nosotros ponemos muy el mestizaje cultural el mestizaje lingüístico y le damos también mucho valor a la pervivencia de todas las lenguas a seguir manteniendo esas lenguas

pues han perdido nuestros euskalkis pues porque de alguna manera tampoco hemos sido capaces de cuidarlos de transmitirlos y de generar esa transmisión

generación por tanto sin ningún ánimo tampoco de imponer nuestra lengua nuestra cultura sino todo lo contrario con el ánimo

ofrecerla para que sirva como herramienta de cohesión también queremos que eso sirva o que las otras culturas otras lenguas sirvan para cohesionarnos

por supuesto que vamos a votar a favor porque entendemos que el modelo que hoy podemos ha puesto encima de la mesa tomando como referencia ese estudio que se ha hecho en gipuzkoa es perfectamente extensible a nuestra comunidad y sin duda servirá como herramienta para todos y todas